eskuragarri dago beste hainbat ez aipatzearren no obstante a pesar de estar en cabeza en lo que a administración digital se refiere

creemos además y somos conscientes de que el gobierno vasco seguirá reforzando sus políticas públicas

en este ámbito una muestra de ello es la campaña realizada recientemente en torno a la administración

que realizan las personas usuarias de estos servicios querríamos preguntarle señora garamendi
cómo miran usted y su departamento al futuro más próximo en el ámbito de la administración digital eskerrik asko aldez aurretik eskerrik asko

los datos hablan por sí mismos en dos mil veintiuno se ha incrementado en un veintidós por ciento

respecto al mismo periodo del año dos mil veinte un sesenta y tres por ciento los accesos a la sede electrónica un ochenta y ocho por ciento

al alza los servicios digitales han pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana esto es así sobre todo por la confianza que transmiten

ágiles y útiles sino que son además seguros la seguridad es el eje principal sobre el que pivotan y deben pivotar todos los servicios digitales en este sentido es imprescindible el trabajo que se realiza en el ámbito de la identidad digital

con la emisión de certificados que permiten realizar trámites con la administración los certificados más conocidas en la tarjeta ciudadana la bak

en el año dos mil veintiuno se ha triplicado el número de identidades digitales emitidas más de la mitad de la población mayor de dieciséis años

quisiera aprovechar esta ocasión para darles cuenta de la evolución que se está realizando precisamente

una tecnología basada en la inteligencia artificial hoy en día para poder obtener una bakq es necesario identificase previamente de manera presencial pues bien en pocos meses sin embargo será posible realizar este trámite sin necesidad de desplazarse gracias a la biometría

consiste en que a través de la cámara de nuestro móvil tablet ordenador se medirán nuestros rasgos biológicos o características físicas

así se garantizará que somos los titulares del documento presentado actualmente ejie ya ha testado esta tecnología

todo ello son pruebas fehacientes de que euskadi se encuentra en un estado de madurez

según reflejan los datos del índice de economía y sociedad digital estamos por encima

y además ocupamos el tercer puesto entre los países líderes en conectividad más del noventa y seis por ciento de la población de euskadi cuenta con acceso a

a afrontar en los próximos años retos que también son extraordinarios este país necesita un acuerdo político amplio que vaya más allá del presupuesto un acuerdo que dé certezas a la gente que marque nuestra respuesta a los retos colosales que tenemos como sociedad

a la altura de lo que exigen las circunstancias que es capaz de abrir un diálogo que no se limite a mover tres o cuatro partidas presupuestarias un diálogo sincero

esas grandes cuestiones y esos grandes retos que le citaba entre los cuales

dos mil veintidós serán claro está un elemento central a debatir espero que su respuesta y su voluntad sean positivas eskerrik asko

aurrekontu asmoa el compromiso del gobierno por lo tanto señora iriarte es firme para abordar con realismo

estamos abiertos a explorar y a mejorar el actual proyecto vamos a aprovechar la oportunidad que nos ofrece la solvencia de nuestras cuentas públicas y la suspensión temporal de las reglas fiscales de la unión europea este año y el que viene contamos con más recursos disponibles para reforzar las políticas sociales y relanzar la inversión pública vamos a acelerar la transición tecnológica y digital
energética y medioambiental social y sanitaria eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

consejeros consejeras señorías buenos días buenos días consejero hace mes y medio compareció usted en este parlamento para dar cuenta de las ayudas directas que concedía su departamento en la fase de resistencia frente a la pandemia

económica y al mismo tiempo mantener el empleo de los sectores más afectados por esa crisis de la covid diecinueve como eran el sector de la hostelería del comercio y del turismo en aquella comparecencia en la que hablaba de esas ayudas de más de ciento catorce millónes de euros y en las que

en aquella comparecencia comentaba usted las líneas de bonos al consumo como

de reactivación económica y el pasado veintisiete de septiembre se publicaba en el boletín oficial del país vasco una orden de su departamento

la segunda edición del euskadi bono denda y se convocaba dicho programa un programa para la reactivación del pequeño comercio local y que pretende incentivar el consumo tanto en establecimientos del sector comercial como de servicios relacionados con la actividad comercial urbana en euskadi este programa que cuenta con la colaboración

la participación de eudel y también con el apoyo del propio sector del comercio de euskadi pretende por parte de su departamento una inversión

para sacar adelante más de cuatrocientos sesenta mil bonos

servicios relacionados con la actividad comercial urbana y se pretende un impacto económico

de catorce millónes de euros en la actividad económica por lo tanto un programa

responsable sostenible además del apoyo al pequeño comercio local y ese programa presenta una serie de novedades muy interesantes porque en cuanto a la edad de las personas que pueden adquirir dichos bonos a partir de los dieciséis años también el número de bonos que se pueden canjear por personas se incrementa en fin una serie de circunstancias de novedades que plantea esa segunda edición del programa euskadi bono denda que

económica por la que parece que empezamos a transitar queríamos conocer la valoración que hacía el consejero de turismo comercio y consumo
respecto a esta segunda edición del euskadi bono denda muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

gracias señora presidenta egun on buenos días efectivamente este miércoles veintisiete
daba comienzo a la segunda edición de la campaña de estímulo al consumo

pues bien una vez analizados los resultados de la convocatoria anterior tanto

conjuntamente con el sector concluimos el buen funcionamiento y la acogida de la iniciativa

la primera de las decisiones ha sido aumentar la cuantía destinada desde el departamento precisamente por esa buena acogida y valoración del sector por ello aumentamos la aportación del departamento desde los tres a los cuatro coma siete millónes de euros además como en ocasiones anteriores hemos abierto el programa a otras instituciones en colaboración con eudel si bien somos conscientes de que algunas de ellas ya habían sacado sus propias convocatorias de bono hemos contado hasta ahora con la adhesión de ayuntamientos

cuyas aportaciones han sumado medio millón más hasta un total de cinco coma uno millónes de euros

la segunda de las novedades es la de incrementar el número de bonos por persona de cuatro a cinco

una tercera novedad consiste en bajar la edad de uso del bono desde los dieciocho a los dieciséis años con el objetivo

y atraerlo hacia este consumo de cercanía la cuarta novedad como respuesta a las peticiones del sector ha sido

el bono denda en dos plazos de canje del bono para evitar que coincidan con el periodo navideño hasta el cinco de diciembre podrán utilizarse los bonos en esta primera fase y el segundo período se iniciará el diez de enero

porque afecta directamente a la tipología y número de establecimientos que podrán utilizarlo hemos incorporado servicios relacionados con la actividad comercial urbana como salones de peluquería e institutos de belleza

servicios fotográficos de fotocopias y de marcación y establecimientos de reparación de distinta naturaleza pues bien tras dos días desde el inicio de la campaña de euskadi bono denda podemos adelantar que esta segunda edición está teniendo una gran acogida primero por los comercios ya que se han adherido en torno a cuatro mil quinientos que son

lo constituyen los relacionados con la moda textil y calzado que como bien saben

más afectados durante la pandemia y el segundo motivo por el que podemos concluir que la convocatoria está siendo un éxito es por la respuesta de la ciudadanía en estos dos días

es decir un veinte por ciento del total en resumen

un aumento de la dotación cinco coma uno millónes de euros para todo euskadi de los cuales cuatro coma siete los aporta el departamento además hemos ampliado la tipología de establecimientos que pueden unirse y contamos con más de cuatro mil quinientos establecimiento adheridos un incremento del cincuenta y cinco por ciento

que pueden aumentar notablemente en el caso de que algunos ayuntamientos hagan sus aportaciones y aumenten esta cuantía

puestos en circulación por lo que podemos valorar este inicio de campaña como un éxito y esperamos que tenga un impacto económico de más de quince millónes de euros en definitiva queremos que estos bonos sean un incentivo al consumo responsable y un consumidor sensibilizado

de nuestra economía unos bonos que puedan ayudar tanto a los comerciantes como a los consumidores y que en esta primera fase pueden utilizarse hasta el cinco de diciembre

aurrekontu espantsiboak ezartzea aboga realmente su gobierno

que sea expansivo y que permita que apuntale la recuperación económica eskerrik asko

la idea de que seiscientos millónes de ampliación sobre el presupuesto que salió de esta cámara

yo creo que el presupuesto de gasto tendría que ser íntegramente o desde luego en mayor medida aprobado en esta cámara

es que en su momento era de prever también que el mayor económico de nuestra historia reciente servicios públicos llegados al límite que el presupuesto

una cosa así porque claro cómo de compatible es por ejemplo pensar en el presupuesto más expansivo de nuestra historia con

su trabajo su puesto de trabajo es ciertamente contradictorio hay otros datos llamativos también

para el dos mil veintiuno es un incremento que es modesto si lo comparamos con el batacazo del nueve coma cinco por ciento del pib

ese aumento es en términos nominales porque en términos reales

de una reducción del gasto en este año de las administraciones públicas

creemos que dificulta la recuperación económica y si hablamos de las inversiones también se nos está hablando de un aumento de las inversiones importante

del presupuesto anterior son que apenas superan el cincuenta por ciento

es lo que se está previendo en este incremento de las inversiones

invertíamos antes de la crisis del dos mil ocho en fin

una buena noticia el aumento de la inversión pública pero tememos que todavía siga siendo insuficiente creemos que tenemos que afrontar debidamente

volver a recuperar las tasas de empleo existentes antes de la pandemia y afrontar con éxito el proceso de transformación de nuestra economía y esto solo se consigue con un presupuesto expansivo como el que hoy hemos enviado a esta cámara o hemos depositado en esta cámara señora gorrotxategi usted hacía referencia también al déficit y la deuda

tanto para el ejercicio dos mil veintiuno como para el dos mil veintidós en el seno de la comisión mixta del concierto económico contamos con recursos para transformar nuestro modelo económico y de desarrollo en la línea que marca la agenda dos mil treinta debemos lograr una economía más tecnológica más verde y más social

esto es en las pequeñas empresas en la especialización inteligente en energía

es expansivo en la transición energética hacia las energías renovables con proyectos como el corredor del hidrógeno las baterías de estado sólido

y en políticas de empleo como palanca para la integración y el equilibrio social en salud y en educación expansivo en prestaciones de la renta de garantía de ingresos ayudas de emergencia social lucha contra la pobreza energética que crece un cuarenta por ciento

de juventud o de igualdad ofrecemos un marco presupuestario expansivo para un crecimiento sostenible y justo que contribuye a impulsar la recuperación y la transformación de la economía

la semana que viene presentaremos el proyecto al detalle estamos dispuestos a escuchar a recibir sus aportaciones y si están dentro del principio de realidad y de nuestras competencias incorporarlas para fortalecer un presupuesto clave para el relanzamiento económico y social de euskadi también en esta década

no hay vetos ni exclusiones ni líneas rojas solo hay voluntad de fortalecer este presupuesto clave para el relanzamiento económico y social de euskadi tenemos tiempo
y tenemos disposición la puerta está abierta eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera carlos iturgaiz angulo

la semana pasada asistimos a una mascarada protagonizada por otegi lo recordará en la que terminaron participando buena parte de las fuerzas de esta cámara

organizó una representación en aiete dirigiéndose a las víctimas del terrorismo pareciendo que eta hubiera sido un fenómeno natural y no una maquinaria

solo los socialistas sus socios lehendakari saludaron con alharacas tal declaración en la que lo que le importaba era lo que le faltaba

el reconocimiento de que el terrorismo careció de cualquier legitimación de la injusticia del daño causado y tercero de la condena de eta usted mismo lehendakari

se expresó en términos exigentes como hicimos otras fuerzas políticas el cinismo de la declaración de otegi quedó claro en pocas horas en eibar

sin máscara ofreciendo su verdadero rostro desarrolló de un modo descarnado la fórmula presos por presupuestos porque en bildu

un mínimo ético en relación con el terrorismo de eta y todo es oportunista y todo es instrumental rizando el rizo la mascarada terminó con todos juntos y en manifestación en san sebastián con algún nacionalista catalán de artista invitado

pnv incluido por cierto lehendakari como sabe y es decir la más absoluta incoherencia

pero lo preocupante es el peso que desde el gobierno vasco su gobierno se concede a bildu en cuestiones fundamentales y el modo en que se legitima a quienes no condenan a eta que

seamos claros dejemos las máscaras a otros hay temas fundamentales en los que el criterio de su gobierno es primar acuerdos con bildu parece parece ser por ejemplo en el impulso de ese nuevo estatus que busca devolvernos a un siglo diecinueve que nunca existió

la reforma de la educación parece que también se quiere hacer de la mano de bildu para dar otra vuelta de tuerca

a lo que ya es un fracaso palmario según los propios informes de su gobierno del gobierno vasco por eso le pregunto mantendrá su criterio de primar la negociación con bildu en asuntos
que son claves para el futuro de todos eskerrik asko iturgaiz jauna lehendakari jauna zurea da hitza

claro que existía el diecinueve y el catorce y el uno antes de cristo usted fue claro ante la declaración de otegi ahora le pedíamos coherencia

pero que sigue sin llegar a la democracia lehendakari porque eso exige romper con su pasado y lo coherente lehendakari es construir el futuro en términos de tolerancia y libertad un país de todos

la definición de nuestro marco de convivencia como sociedad democrática en manos de un partido que no condena el terrorismo ni rompe con la historia criminal de eta y por otro lado lo coherente lo sabio

con la que se formen nuestros hijos y nuestros nietos se ha filtrada

de cualquier referencia ética o convicción democrática

es decir para quienes la educación es también instrumental al servicio de sus propios fines como usted mismo dijo bildu no ha hecho y eso son palabras suyas una reflexión sobre la violencia que causó el dolor

en coherencia con ello lehendakari le pedíamos y le pedimos una reflexión sobre sus alianzas y prioridades al negociar temas que afectan al futuro de todos los vascos y por eso

la preferencia por lo tanto señor iturgaiz para alcanzar acuerdos no la define el gobierno que cuenta con mayoría absoluta sino la práctica parlamentaria de cada grupo de la oposición en su caso esa práctica nos demuestra que en cuestiones clave como la ley para la gestión de la pandemia se lo cito nuevamente la adecuación del presupuesto dos mil veinte a la pandemia o el presupuesto dos mil veintiuno su grupo ha unido sus votos a los de eh bildu para hacer oposición al gobierno vasco

y me parece legítimo que lo hagan esos posicionamientos comunes de su grupo con eh bildu no han impedido que el veintiuno de octubre por ejemplo todos los grupos salvo eh bildu suscribiéramos aquí o planteáramos aquí mismo el siguiente compromiso y cito textualmente

nítidamente expresado que ningún argumento puede ser invocado para minimizar justificar o legitimar la violencia de eta ni ninguna otra violación de los derechos humanos

y no diluiremos esa posición en materia de memoria crítica del pasado le reitero que en las cuestiones que son clave para el futuro de la sociedad vasca

sin establecer a priori criterios de preferencia por nuestra parte también estamos abiertos a lo que ustedes denominan coincidencias de voto ahora bien

en todo caso los temas que usted cita esto es autogobierno educación y convivencia son claves para el futuro de euskadi y nuestro criterio va a seguir siendo tratar de ampliar y fortalecer los acuerdos también son claves los presupuestos

son cuestiones en las que vamos a trabajar las coincidencias son cuestiones que nos va a permitir comprobar la voluntad real de alcanzar acuerdos por parte de este gobierno y también

buruz martínez andrea zurea da hitza gracias señora presidenta buenos días lehendakari consejeros señorías

no con quien naces sino con quien paces señor urkullu su socio de gobierno no es fiable y por extensión su gobierno tampoco y me voy a explicar brevemente

que la violencia de eta nunca debió producirse nada creíble usted también lo reconoció y evitó su euforia y pidió acciones concretas pero el pse

llegando a calificar el gesto de inflexión sabiendo que de eso no había absolutamente nada cirugía estética para avanzar en el blanqueamiento de un socio potencial

les explicó que había que hacer movimientos para sacar a los presos de la cárcel y que para ello necesitaban a sánchez dos años más o si era posible seis el pse seguía a lo suyo ante el árbol de gernika aplaudiendo la redención de la izquierda abertzale y también atribuyéndose la victoria sobre eta

la ley de partidos los jueces fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que tanto tuvieron que ver con la desaparición de eta empieza a rondar la sospecha de que hay algo entre pse y la coalición que dirige dudas que además se van convirtiendo en certezas cuando eh bildu bloquea una declaración de este parlamento contra la violencia de eta y por fin llega al clímax de la mano de informaciones periodísticas que detallan todo el plan

para entrar entre otras cosas a allanar el camino a posibles pactos en madrid con el señor sánchez y en el país vasco para sacarles a ustedes del gobierno en próximas legislaturas

se escuchan voces a favor de nuevas alianzas en las que el pnv no entraría

de ser limpia dudo que sea fácil digerir que su socio de gobierno esté tonteando con su principal rival en las urnas para desalojarle a usted de la lehendakaritza todo esto

después de saber que su pareja juega partidas cruzadas y que lo hace con opciones políticas que aún homenajean a etarras y se resisten a deslegitimar la violencia de eta mantienen esas aparentes buenas relaciones o algo ha cambiado tras saberse prescindibles si en las próximas elecciones confirman la posibilidad de nuevas alianzas le preguntaría también qué sabe usted de todo esto

para seguir blanqueando a la izquierda abertzale y así seguir allanando el camino a pactos
y allí recuerde allégate a los malos y serás uno de ellos eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea lehendakari jauna zurea da hitza

señora martínez yo no sé si le ha traicionado el subconsciente porque la declaración de aiete

fue el dieciocho de octubre y no el dieciocho de julio como usted ha escrito en su pregunta es un lapsus que me preocupa señora martínez

en todo caso las relaciones dentro del consejo de gobierno gozan de buena salud eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna martínez

desgraciadamente no lo tenemos dicho esto los pactos de gobierno tienen sus tiempos señor urkullu y ustedes aún están en la luna de miel con alguna fricción pero aun compartiendo intereses

por la necesidad de marcar perfil propio la acción de gobierno se resentirá y usted se verá obligado a navegar en aguas revueltas yo no pondría la mano en el fuego por un socio de gobierno como el suyo lo que no significa que opine que el pnv es el mejor para esta región todo hay que decirlo por ejemplo allí en madrid hemos aprobado usted habla de la ley antipandemia esa que muchos grupos

no le voy a dejar que me diga lo mismo que al pp porque nosotros tampoco lo hemos aprobado hemos votado como bildu pero la diferencia es que lo hemos llevado al tribunal constitucional eskerrik asko martínez andrea

señora martínez la pregunta y la justificación llevan su firma

muy gracioso sí el dieciocho de julio no fue nada gracioso señora martínez

y lo importante de la relación es el resultado práctico y lo cierto es que

porque sobrepasan los límites de lo verdadero de lo natural de lo normal de lo justo de lo conveniente

le puedo ofrecer tres pruebas concretas de la buena salud de las relaciones entre quienes integramos el consejo de gobierno y los grupos parlamentarios que nos apoyan también en el ámbito que hoy se ha referido usted

ejemplos recientes del último mes hemos aprobado el plan udaberri dos mil veinticuatro el plan estratégico del instituto gogora para los próximos cuatro años

segunda prueba la declaración aprobada el diecinueve de octubre en el consejo de gobierno señora martínez esta declaración refleja el sólido consenso en relación con el significado del décimo aniversario del fin de la violencia de eta su contenido

una mirada al pasado en términos de condena radical de la sinrazón

las ochocientos cincuenta y cuatro víctimas mortales y los miles de personas heridas secuestradas amenazadas coaccionadas o extorsionadas son reflejo

una mirada también en términos positivos porque caminamos con determinación y paso firme en la buena dirección el reconocimiento legal institucional social

y el haber recuperado como sociedad la confianza en nuestras propias capacidades representan avances significativos y una mirada al futuro mirada esperanzada y comprometida

la dignidad de la persona la protección y la garantía efectiva de los derechos humanos

o la diversidad todas y todos nos sentimos reconocidos en estos principios y valores esta fue la declaración de todo el gobierno tercera prueba

en el que reiteramos nuestra coincidencia sobre aquello que consideramos básico en materia de memoria crítica sobre el pasado reitero que nos debemos a un programa y que lo vamos a cumplir porque compartimos un principio ético irrenunciable no hubo y no hay ninguna razón política que pueda anular la dignidad la integridad y el derecho a la vida de las personas eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta muchas gracias señorías señor lehendakari

señorías miren la seguridad ciudadana es un elemento fundamental que garantiza la convivencia en una sociedad democrática el libre ejercicio de los derechos y libertades por parte de todos

a pesar de las declaraciones de su departamento que yo las calificaría de autocomplacientes incluso a veces triunfalistas

a la seguridad ciudadana están creciendo de manera preocupante me centro hoy solo en los que han sucedido en los que han acontecido en las últimas semanas

dos detenidos por sendas agresiones sexuales en zarautz y zumárraga

una agresión por parte de un grupo de chicos a una joven aquí en álava en vitoria dos detenidos por robo y agresión dos hombres ingresan en prisión por agredir sexualmente a otro en la florida dos peligrosas bandas vizcaínas que roban armas

el de hoy noventa y siete lunas y cinco trenes fuera de servicio

por parte de un grupo y ya los vecinos de bilbao ayer desesperados salieron a la calle para pedir

la conclusión es que necesitamos señor erkoreka y se lo digo con total sinceridad que el gobierno reaccione necesitamos que el gobierno reaccione que ejerza sus competencias que para eso las tenemos en seguridad ciudadana y necesitamos para ello una policía altamente motivada coincidirá conmigo en que este libre ejercicio de los derechos que es

requiere de una policía bien dotada organizada bien formada

son tres grandes áreas señor erkoreka que yo creo que aquí podemos coincidir medios y organización formación y motivación

le voy a hacer una pequeña radiografía medios y organización

yo no lo era de que la ertzaintza no tiene unidad antidrogas la única quizá comisaría que tiene capacidad de procesar un caso duro difícil que tenga que ver con esto es la comisaría de bilbao

las dotaciones móviles por ponerle un ejemplo señor erkoreka yo creo que necesitan una renovación urgente sabe usted que quitando en bilbao y alguna otra excepción de alguna otra comisaría tienen que ir en coches en coches patrulla o enviar directamente a la brigada móvil cuando hay una cuando hay un asunto de orden público en este momento tenemos siete mil ertzainas como usted sabe un poquito más siete mil cuarenta creo mil por debajo de lo que debería ser y

son de la escala básica es decir porque los puestos directivos están todos cubiertos y me dirá y tiene razón oiga señor gordillo se está formando ahora una promoción saldrán quinientos seiscientos que ingresarán

se ha suprimido aquí en álava recientemente la patrulla verde los grupos gama y ahora hay que recurrir directamente al grupo de ocho personas que hay en erandio como usted bien sabe

yo creo que por más que se intente negar la evidencia la estructura de nuestra policía señor erkoreka no es adecuada

y esto hace que al final acabemos siguiendo el esquema de una policía municipal

policías municipales tenemos y son muy competentes y efectivas pero lo que se necesita es tener una policía como la ertzaintza bien dotada bien formada y bien motivada formación está judicializada la última ope está judicializado la última ope y eso que le avisaron ya los sindicatos mayoritarios

en términos económicos y luego hay muchos jóvenes que están formando en la academia y que no van a lograr su plaza esto ya es grave por la frustración que causa la inseguridad pero es que además se está formando en técnicas de seguridad se está formando se está enseñando cómo funciona la ertzaintza internamente compartiendo digamos las entrañas de nuestra estructura de seguridad a personas que al final no se van a acabar integrando en la ertzaintza con lo que eso puede suponer no hay prácticas de tiro obligatorio

cualquier vigilante jurado tiene prácticas obligatorias de tiro y en la ertzaintza no hay prácticas obligatorias de tiro van a acabar acudiendo

que les ayuden perdonen que ya lo han hecho que la ertzaintza ya recurrió al ministerio de interior

en fin la academia en todo este año no ha hecho ni un solo curso de formación que yo sepa espero que me corrija pero creo que no ha hecho ni un solo curso no me diga que es por el covid porque estos cursos ya se habían planificado previamente

somos una sociedad verde somos una comunidad verde y ustedes creo que son un gobierno verde no

ningún curso no se forma a nadie en medio ambiente la motivación los efectivos de nuestra policía señor erkoreka están muy desmotivados tiene usted a los

los dos sindicatos que suman el ochenta por ciento recurren el decreto del sistema de desarrollo profesional de la ertzaintza

dimisión de la responsable de recursos humanos en fin el ochenta por ciento

el decreto sobre desarrollo profesional hay muchas diferencias retributivas

que valorar también pero oiga lo que yo creo que no es de recibo es que cuando hay operativos conjuntos

cuando a un policía local se le está pagando hasta sesenta y cinco euros la hora hasta sesenta y cinco esto por qué es porque las policías municipales que dependen de los ayuntamientos

en cambio en el caso de nuestra policía pues la verdad es que la diferencia retributiva yo creo que es bastante grande pero bueno sin entrar ahora en este tema el decreto ciento ochenta barra dos mil uno

es un decreto que ha logrado la práctica unidad sindical en su contra aquí le dicen lo he leído en la prensa y analizado el decreto y yo creo que tienen mucha razón se utilizan ciertos factores que no tienen una alteración equitativa pero sobre todo no se justifican

capacitación cualificación y luego la implicación y compromiso y aquí hay un tema particularmente preocupante para profesionales de la seguridad y es que

que puede ser un problema en la mano lo que sea que le impide manejar el arma reglamentaria pues se tiene que coger una baja y luego en cambio estas bajas

le penalizan a la hora de ir ascendiendo de niveles y a la hora de ir accediendo también a ciertas mejoras retributivas me dirán hombre señor gordillo no ha salido el decreto es que hay un anexo al final donde dice que hay una serie de enfermedades ya pero ahí no están y las enfermedades habituales las enfermedades habituales de los profesionales de la seguridad no están en esa lista las enfermeras habituales de los profesionales de seguridad

trabajara de otra manera yo creo como le decía antes señor erkoreka que creo sinceramente

se lo digo sinceramente desde aquí desde la tribuna creo que deberían rectificar y reformar este decreto antes de que la justicia les quite la razón

mucho más finalmente un ejemplo de cómo se han llegado

y un recuerdo para esas personas yo todavía me acuerdo de ese grupo de siete intendentes

no sé si los socialistas lo recuerdan estas personas como todas las personas pues tenían su ideología sus preferencias personales sus gustos pero eran ante todo profesionales de la seguridad

la máxima dirección de la ertzaintza ellos aceptaron por responsabilidad porque son profesionales de la seguridad y porque eran conscientes de su papel

los mandaron a despachos prácticamente sin funciones alejados de cualquier responsabilidad ya solo quedan tres en activo

que quedan en activo olvidados apartados apartados como un juguete roto y que han sido

y sobre todo les envío mi reconocimiento por su profesionalidad

y con este panorama le interpelo hoy con mucho interés y mucha preocupación y le pregunto cuáles son los propósitos de su departamento en relación con el desarrollo de la carrera profesional

he leído con interés el texto escrito de su interpelación y he podido comprobar en una primera aproximación que aunque en la parte introductoria toca usted muchas teclas

de la motivación de la ertzaintza de los episodios del verano con agresiones a la ertzaintza y demás después afortunadamente en la parte en la que tiene que formular exactamente cuál es el foco de interés

y nos habla concretamente me pregunta concretamente sobre los propósitos del gobierno en relación con el desarrollo de la carrera profesional de la ertzaintza este es por tanto su foco de interés de este conflicto

he podido comprobar que en su intervención abre de nuevo el abanico e incorpora no solamente los temas que aparecen citados en el texto escrito sino además otros temas con afirmaciones que yo en fin tendría que contestar o podría objetar muchas de ellas yo niego rotundamente

declaraciones autocomplacientes o triunfalistas en relación con la gestión de esta área o la situación de la seguridad en euskadi

ni es mi vocación en absoluto el de hacer ese tipo de declaraciones me habla de los medios de la organización de la motivación

de cambiar de arriba abajo la estructura de la ertzaintza me habla de los efectivos no sé si

de la plantilla están acordados bilateralmente en la junta de seguridad y están sujetos

todas encadenadas sin precisiones al respecto aunque con muchas incorrecciones habla de la ope recurrida en fin como muchos actos administrativos se recurren sin ningún tipo

me habla de las prácticas de tiro cuando todos los años desde eh bildu me reprochan en el presupuesto porque hay demasiadas dotaciones para municiones si no hay prácticas de tiro la munición dónde se gasta exactamente

hay una declaración de un líder de un sindicato que ha hecho una declaración una sola vez tampoco lo ha repetido porque me ha parecido poco afortunada pero no es la ertzaintza la que pide acogerse al ministerio de interior en fin hay muchos temas que ha tocado a usted que requerirían seguramente interpelaciones monográficas sobre cada una ellas por tanto me voy a centrar en la que parece ser que centra su atención en este momento el desarrollo profesional de la ertzaintza

sí me llamó la atención en su interpelación el texto escrito de la interpelación el hecho de que considerara que el decreto que tiene que ocuparse de la regulación del desarrollo profesional de la ertzaintza lo diga

que forma parte este decreto de las normas pendientes de aprobación hombre seguro que esta semana usted ha hecho los contrastes pertinentes se ha hecho las comprobaciones necesarias a este respecto y se ha dado cuenta

que se aprobó el veinte de julio hace ya tres meses que se publicó en el boletín oficial de la comunidad autónoma el treinta de julio y que a partir de entonces hemos sido particularmente diligentes en dotar de contenido y en desarrollar todas las previsiones y contenidos del decreto hasta el extremo

los primeros ingresos que van a experimentar las y los ertzainas acogidos al decreto

lo van a recibir en la nómina de noviembre en la próxima van a recibir ya

y en la nómina de diciembre la valoración del dos mil veinte fíjese hasta qué punto

notable e importante a este aspecto digamos del desarrollo de la ley de policía no quiero decir con esto que con anterioridad a la

por el equipo al que yo encabezo no se haya actuar con diligencia porque

acometieron muchas funciones entre otras cosas se llevó a cabo el texto refundido durante ese periodo que era uno de los mandatos de la ley pero también se elaboró

un proyecto de decreto regulando el desarrollo profesional porque el veinticuatro de julio de dos mil veinte

un proyecto de decreto en relación con esta cuestión por tanto es verdad que la ley del año dos mil diecinueve decía que los desarrollos reglamentarios se llevarían a cabo

pero no es menos cierto que en el plazo de un año hombre ocurrieron tantas cosas probablemente imprevisibles por parte de los legisladores en aquel mes de junio del año dos mil diecinueve que alteraron todas las circunstancias subvirtieron el régimen de trabajo y el rendimiento de todos los sectores y de todos los ámbitos públicos y privados

el departamento de seguridad concretamente en relación con el decreto de desarrollo profesional el único que no iba a acusar de alguna manera las incidencias y los efectos de la pandemia que entre otras cosas supuso que se acordó con norma de carácter básico la suspensión y la paralización de todos los términos y plazos administrativos en la tramitación de los procedimientos correspondientes bien dicho esto

el sistema como bien sabe usted que ya está aprobado está en pleno desarrollo descansa sobre dos fases y dos periodos las fases son

y los dos periodos son el de implantación que termina en diciembre del año dos mil veintitrés y

nos encontramos ahora en el periodo implantación porque la norma está desplegando todos sus efectos el encuadramiento se convocó el dos de agosto

se publicó el trece de agosto estos son los términos del boletín oficial y ya a estas alturas se han producido siete mil doscientos setenta y ocho solicitudes ya se han tramitado

que corresponden a personas que no cumplen en principio los requisitos insisto

la mayoría de estas personas no cumplen el mínimo de cinco años de antigüedad exigido para poder acceder a la carrera profesional aunque pueda haber supuestos excepcionales que estén excluidos de este tema y se están analizando ahora en las alegaciones que han formulado las personas que consideraban que tenían que hacer impugnaciones a este respecto

y han superado el encuadramiento ya seis mil ochocientos treinta y dos solo seis personas han quedado excluidas solo seis personas han quedado excluidas del proceso de encuadramiento probablemente porque se trata de personas

el cumplimiento de los baremos recogidos en la propia norma o

expedientes disciplinarios que como podría usted imaginar la norma

acceder con facilidad a la carrera profesional estamos ahora en fase de alegaciones

del primer período de manera que las valoraciones correspondientes al año dos mil diecinueve se satisfarán en la nómina ya del mes de noviembre por tanto aquí insisto se ha actuado

dice usted que los sindicatos se han opuesto casi unánimemente al acuerdo mire un sindicato que se apeó desde el principio

eran partidarios de un modelo de desarrollo profesional radicalmente distinto y que por tanto no podían compartir nada de lo que se aprobó en esta cámara

se aprobaron en la quinta modificación de la ley de policía aquí en esta cámara el diecinueve de junio

perdón el veintisiete de junio de dos mil diecinueve por tanto hubo un sindicato que se excluyó

intensas durante muchos meses primero bilaterales y después multilaterales

porque los sindicatos que continuaron en la negociación quisieron que se celebraran mesas y se celebraron hasta seis

mayo y junio todo esto culminó en un consejo de la ertzaintza

y las valoraciones de los sindicatos de los que votaron sí y de los que no votaron sí todas eran positivas todas valoraban positivamente

otra cosa es que como estamos en año electoral haya sindicatos que tácticamente estratégicamente tengan interés en situarse digamos en una posición crítica con respecto al gobierno porque van a

con total legitimidad cada uno de ellos fija su posición usted me habla de las retribuciones y del marco comparativo de retribuciones con otras policías como no tengo tiempo de intervenir ahora y de aclarar sobre ese particular

pero solo le pediría que no incurriera fácilmente en

que como usted bien sabe está viene acotada por la jurisprudencia del tribunal constitucional

que carecen de fundamentación objetiva y razonable y creo que aquí las diferencias de trato que puedan existir

en esta cámara supongo que usted eso no lo pondrá en cuestión eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gordillo jauna zurea da hitza

sobre la interpelación en la que efectivamente figuraba como pendiente de desarrollo un decreto que ya estaba aprobado y que yo entiendo que su equipo rápidamente se dio cuenta yo me di cuenta al final cuando la presenté pero mire la dejé y por qué la dejé mire porque la pregunta que yo le hice

aquí tiene usted un enlace donde lo puede comprobar a fecha de ayer ayer me meto en esa página y el decreto sigue como pendiente de desarrollo

actualice usted su propia página web también yo creo que esto nos viene a los dos a mí para ser más cuidadoso no le digo que no y para mirar con lupa la respuesta de sus preguntas y yo creo que a usted para poder actualizar las páginas web que yo creo que son fundamentales hoy día mire en cuanto a lo que le he preguntado en la interpelación una policía bien motivada

una policía bien retribuida por supuesto pero una policía de verdad motivada que tenga una formación que tenga posibilidades de promoción que realmente tenga posibilidad de desarrollo profesional y personal la estructura que tenemos impide eso de partida ustedes quieren

el ertzaina para todo es que no aparte es que

tiene que haber un cierto nivel de especialización pero es que le vuelvo a insistir con algunas cosas que le he comentado antes decía usted no oiga es que espero que usted apoye la junta de seguridad ampliada a más de ocho mil ertzainas los efectivos hombre me lo pone muy complicado

me lo pone muy complicado que defendamos que se incremente todavía

haga lo posible por incrementar el número de ertzainas en efectivo en servicio

mire con el proyecto este con el decreto de desarrollo de la carrera profesional que es cierto que se viene

lo conocemos bien si es que le tuvimos que pedir nosotros por vía de solicitud de información

yo no he venido tanto a yo le he puesto una serie de ejemplos en el tema retributivo que me parecen importantes pero es que se ha metido usted al final en el barro dice no es que las diferencias retributivas solamente

cuando no tengan un fundamento objetivo y razonables o sea en un operativo conjunto

que la diferencia retributiva en ese caso tiene un clarísimo fundamento hombre yo creo que por ahí no debemos ir yo no le estoy diciendo

que lo podría hacer por cierto establezca una equiparación al máximo

tenemos todavía más normas pendientes de aprobación señor erkoreka y hombre estaría bien que cuando las vaya a preparar

y sobre todo hombre me habla usted de los sindicatos pero bueno pues sí que todos los sindicatos y luego hay uno

que con ustedes suele acordar las cosas pero que parece ser que tampoco es el sindicato mayoritario vamos yo me he mirado las elecciones sindicales

pues que los sindicatos lógicamente pues que están digamos empezando a movilizarse

la fecha programada y en tema de organización sindical señor erkoreka estoy convencido de que usted está de acuerdo conmigo

todos los sindicatos tienen que poder entrar en arkaute si hay un sindicato que puede entrar todos los sindicatos tienen que poder entrar a realizar la actividad que en ese caso se les pueda permitir realizar a algunos de ellos yo simplemente acabo como empecé señor erkoreka creo que es necesario

le he puesto ejemplos le he puesto ejemplos de que es necesario una policía mejor dotada una policía más motivada y una policía con mayor formación

y lo que le pido como gobierno lógicamente es que nos dé respuestas que nos dé respuestas y que lleve a cabo medidas para corregir estas cuestiones porque la seguridad es tan importante que el resto de nuestros derechos depende de que se cumpla este primer derecho y es una pena señor erkoreka porque yo creo que en materia de seguridad nuestros grupos podríamos tener

y la verdad es que no entiendo la verdad es que no entiendo por qué tratan así a la ertzaintza no entiendo por qué

intentando que la ertzaintza sea una policía pues prácticamente equiparada a la municipal que esto no es malo en sí mismo
pero que ya hay policías municipales necesitamos una policía especializada muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna erkoreka jauna zurea da hitza

totum revolutum de cuestiones encadenadas sucesivamente que abordan prácticamente todo el abanico de posibilidades de temas y de materias que se pueden abordar el conjunto de ertzaintza fruto sin ninguna duda de alguna conversación que ha tenido usted con alguna persona relevante

anoto en primer lugar la observación que hace a propósito de que la página web no estuviera actualizada muy bien anote usted también la observación en el sentido de que hombre dar por supuesto tres meses después de aprobada una norma que una determinada forma parte de las materias pendientes y que debe utilizar eso como motivo de reproche para una interpelación

de que estamos convirtiendo la ertzaintza en una especie de policía local yo creo que sencillamente es una apreciación absurda

ni por cometido ni por funciones ni por estructura ni por técnicas

no se asemejan más que en una serie de protocolos comunes en los que efectivamente

de ahí que su formación básica sea compartida a partir del año dos mil doce dentro de una academia que ahora integra la formación de ambos tipos de policías me dice que apuesta por una policía más dotada más motivada y con más formación hombre esto es un desiderátum general por supuesto yo como consideración

sí le voy a decir una cosa fíjese en el proceso de negociación del decreto que regula

una en materia de salud una apuesta clarísima en materia de salud con incrementos presupuestarios anuales

y una concreta para formación con propuestas concretas detalladas de paquetes formativos anuales para los próximos años

formación se sumó a esta propuesta del gobierno que atendía requerimientos de

por supuesto que buscamos una

la cuestión de la plantilla mire la plantilla de ocho mil efectivos está acordada en junta de seguridad hace ya años

diario y había que incluir en esa dotación un colectivo importante de efectivos que se iban a ocupar de los servicios de asistencia de custodia de las personas perseguidas afortunadamente este problema ya no es el que era y por tanto

la necesidad de reducir esos efectivos y sin embargo hemos conseguido mantenerlos tal y como están me dice sí pero para que existan los ocho mil tienen ustedes que dar marcha a la academia mire la academia está a tope estamos haciendo convocatorias desde que yo tomé posesión de setecientos

a los que se suman los en este caso van a ser ciento cincuenta de la policía local lo que nos

la capacidad máxima de la academia para poder prestar una actividad formativa normal es de mil que en este caso

juez de lo contencioso en relación con uno de los recursos planteados me habla de los recursos planteados en relación

contra el decreto de desarrollo profesional de la ertzaintza pero fíjese por casualidad el decreto debe ser tan malo tan malo tan malo para quienes lo han recurrido que ninguno de ellos ha solicitado la suspensión cautelar fíjese ninguno y de hecho ya le he dicho que hay siete mil solicitudes prácticamente el cien por ciento de la plantilla

tan malo no debe ser cómo están intentando vender después de hacer una valoración positiva ante la junta de la ertzaintza ante el consejo de la ertzaintza pues quienes están ahora en campaña electoral con toda legitimidad que esto yo no lo voy a por tanto me dice

no es un centro policial más que en lo que afecta estrictamente a los

por lo demás es un centro académico por tanto el acceso de los sindicatos es el de un centro académico no el de un centro policial a los centros policiales todos entran con absoluta libertad pero en un centro académico tienen restringida o limitada

una vergüenza el maltrato al que viene sometiendo el gobierno vasco desde hace años a las trabajadoras de un servicio público tan fundamental y esencial en nuestra opinión como es

nos parece una vergüenza cómo este gobierno viene condenando a una situación

en relación al trabajo tan importante fundamental esencial y diría yo que vital que hacen las trabajadoras de este servicio público que son quienes atienden las llamadas de auxilio muchas veces vitales por parte de la ciudadanía

mileuristas jornadas elevadas con turnos elevados que no cobran turnicidad con falta de una serie de derechos que vienen reclamando desde hace mucho tiempo y por eso nos parece también una vergüenza cómo este gobierno durante mucho tiempo viene ignorando

en nuestra opinión como le digo absolutamente esencial para la ciudadanía pensamos que esto es producto de la política privatizadora de este gobierno que que un servicio de primer orden como este un servicio público se gestione a través del modelo de empresa privada es producto de sus políticas la lamentable situación que vienen denunciando las y los trabajadores desde hace mucho tiempo ahora en poco tiempo van a sacar el próximo pliego si no estamos equivocados y las trabajadoras reivindican qué va a hacer este gobierno para garantizar unas condiciones de trabajo dignas y esa es nuestra pregunta qué están dispuestos ustedes a hacer

que dan un servicio público de primer orden y absolutamente necesario para la ciudadanía puedan tener unas condiciones de trabajo dignas acorde con ese trabajo tan importante que hacen

señor hernández permítame en primer lugar hacer abstracción de las palabras gruesas que ha utilizado usted calificando la actuación del gobierno

no se permitiría a mí lo que se le autoriza o se le tolera a usted

de un error que radica en que toma la parte por el todo fíjese usted me está hablando y yo ya he reproducido

y de tráfico para referirse exclusivamente a las personas que atienden las llamadas telefónicas de emergencias y de tráfico emergencias y tráfico son mucho más mucho más que las personas que atienden las llamadas no son la plantilla como dice usted toda la plantilla

no forman parte por no formar en estricto derecho ni tan siquiera de las plantillas del departamento de seguridad forman parte de las plantillas de la empresa que tiene adjudicado el servicio

eso viene así de tiempo inmemorial no es el proceso de privatización de este gobierno como si fuera una decisión adoptada este año o el año anterior por este ejecutivo o por este gabinete y además la misma situación tienen el noventa y nueve por ciento de los servicios

por todos derechas izquierdas arriba y abajo por todos

y no obtuvieron resultado satisfactorio no consiguieron acreditar que existía una cesión ilegal de trabajadores y por tanto la situación continúa como ha estado siempre no es una decisión de este gobierno en segundo lugar usted sabe seguro que no se le oculta

alterar las condiciones laborales de una empresa adjudicataria de un servicio son francamente limitadas sobre todo cuando se trata de una empresa que opera en un sector en el que existe un convenio colectivo a nivel estatal y un convenio que ha ido incorporando mejoras

últimos tiempos como por ejemplo el de la estabilidad que se garantiza a través de la subrogación de las y los trabajadores en las empresas en el supuesto de que se produzca un cambio en la empresa adjudicataria dicho esto mire hace cuatro años

es posible en el marco de la legislación ya se trabajó con las cláusulas para contribuir a mejorar

y ahora que se está trabajando en la elaboración de los pliegos todavía hay tiempo para esto porque el contrato termina en junio del año que viene

dentro de lo que legalmente es posible y dentro del estrecho margen que a ese respecto permite la ley de contratos de en fin del sector público

hernández jauna zurea da hitza bai eskerrik asko erkoreka jauna no me responde usted a la pregunta

cómo piensan ustedes arreglar su situación y garantizar que tengan unas condiciones de trabajo dignas

son parte de nuestro sistema de emergencias creo que he hablado perfectamente y correctamente y usted además lo sabe

dan un servicio público esencial para ustedes privatización es solo cuando un servicio que anteriormente se daba de manera directa desde la administración pública se privatiza para mi grupo no para mi grupo el mantenimiento de ese sistema a través de la gestión de una empresa privada

es mantener en el tiempo un servicio público que es esencial que no es temporal mantenerlo a través de ese modelo para nuestro grupo desde luego es un modelo privatizador y eso es la política que ustedes practican porque ustedes podían practicar otro tipo de política porque las funciones que están otorgadas para este servicio público corresponden a su departamento le corresponden a su departamento

ideológicas perfectamente legítimas pero que nosotros no compartimos

que este sea el sistema porque el servicio le corresponde darlo a ustedes

de la empresa privada y es un modelo que además les permite a ustedes esto mismo que ha hecho usted hoy aquí esta mañana

con los trabajadores para no dar respuesta de lo que es su obligación garantizar que trabajadoras que dan un servicio público esencial para la ciudadanía tengan unas condiciones dignas y que a través de esas condiciones dignas el servicio público pueda ser dado en buenas condiciones por eso pensamos que su modelo tiene

importantes consecuencias negativas para la sociedad primero las precarias condiciones en las que siguen las trabajadoras y segundo la degradación constante de este servicio público

me lleva usted al debate de los modelos no me dice exactamente cuál es el modelo de qué comunidad autónoma o de qué país le gusta a usted

no tienen nada que tenga que ver ni de lejos con recepción de llamadas en emergencia nada que tenga que ver pero dicho esto fíjese estamos

en las condiciones especiales de ejecución relacionadas con

que veremos luego si pasan la tasa de legalidad en el ámbito de las causas de resolución específica

tercero se cambia la ponderación en la oferta técnica en la oferta económica de manera que se pueda favorecer no garantizar como dice usted el mantenimiento y la mejora de las condiciones laborales se adoptan también medidas para evitar

ofertas a la baja tirando los precios hay algunos mecanismos que permiten hacer esas cosas

y no lo he hecho por ánimo de vendetta ni por

explicar por qué razones euskal herria bildu no está tranquilo ante la gestión del gobierno en estos momentos porque tenemos precedentes en los cuales ustedes no han cumplido su tarea mire

hay propuestas encima de la mesa hay empresas interesadas usted hace bien poco ha revuelto cielo y tierra

está manteniendo un estruendoso silencio con respecto a esta cuestión de la naval

que no conocía del todo los planes de la empresa belga que se ha hecho con los terrenos para continuar la gran

y mantener la capacidad de construir barcos de tamaño grande es imprescindible el mantenimiento

esos terrenos son insustituibles e irrepetibles por su tamaño por su ubicación y su acceso a la ría al mar y posibilitar la construcción naval

si se destruye el equipamiento de construcción naval las gradas

el acceso al mar las naves nunca jamás este país volverá a tener capacidad

y yo diría que incluso cultural de gran importancia por eso le pedimos a su gobierno

de forma clara e indubitable y de forma insistente trasladé a los dueños a los actuales propietarios de ese terreno que para este país es una cuestión estratégica

estratégica y que este gobierno va a poner todos los mecanismos políticos y jurídicos que estén en su mano para garantizar

maximizándola porque es verdad que el mínimo es un cincuenta y uno por ciento pero se puede llegar a más y la actividad naval con las ofertas

sería compatible con otras opciones también de carácter que pudieran ocupar otra parte de los terrenos hay un buen plan otras veces el problema es que nadie quiere invertir hay un buen plan

y yo le pido a usted señora tapia que en otros aspectos es tan ubicua comunicativamente

se ve que no he insistido suficiente aunque creo que sí lo he hecho yo creo que desde el punto de vista

en segundo lugar además de esa propuesta que tiene usted ahí existe más de una propuesta tanto de carácter de industrial naval como de industria de otras características asociadas por ejemplo

y otro tipo de actividades industriales existen más de uno y de dos proyectos es cierto y estamos en conversaciones con la empresa adjudicataria en este momento que su vgp para que esas

en el caso de que hiciera falta que la propia empresa vgp incluso el gobierno tomarán participación si hiciera falta todo eso está sobre la mesa pero como siempre le digo en estas ocasiones

y que tiene que producirse además en ese ámbito de la margen izquierda donde siempre el gobierno ha hecho una apuesta que se puede demostrar a lo largo de los años y también en esta ocasión bueno tenemos que trabajarla

garantizando eso sí que esa actividad industrial se desarrolle en ese ámbito

sí instalaciones importantes sí tiene que haber un proyecto que parece que lo hay tiene que haber inversores para poderlo llevar adelante si se dan todas esas premisas desde luego la empresa adjudicataria en este momento no tiene ningún problema y así nos lo ha trasladado en que esa actividad continúe por tanto vamos a trabajar entre todos para que la margen izquierda en su conjunto y también los terrenos de la naval recuperen

que existió recuperen asociado al mundo naval pero también a otro tipo de actividades industriales y recupere empleo y calidad de vida para la ciudadanía del entorno

sí gracias señora presidenta señora

difícil en los medios de comunicación obtener información y lógicamente pues queremos saber es un plan absolutamente vital para

la próxima política agraria común y el plan estratégico español donde ustedes están trabajando y sí que nos gustaría saber la evolución de su posición hemos

y hemos visto una evolución de su posición de una posición crítica a una posición favorable y

con conocer cómo están las negociaciones en la reunión de la conferencia sectorial de agricultura del pasado veintiuno de octubre que fue telemática fue también el objeto fundamental la nueva pac y el plan estratégico de españa además de la distribución de ciento cuarenta millónes de euros para la sostenibilidad ambiental y fondos

agrícola y ganadero nosotros sí que en ese sentido del plan estratégico y de la pac sí que

usted dirá si se han producido acuerdos ya definitivos en relación con algunos extremos habló de acuerdos

es así la nota de prensa el grueso de los asuntos está cerrado

y pero por otro lado parece que no hay un acuerdo completo en ese sentido todo indica su conformidad señora tapia y yo le pregunto cuál fue su posicionamiento cómo valoró el gobierno vasco en la conferencia sectorial el proyecto de plan estratégico planteado por el ministerio de agricultura y

verdaderamente está pasando no porque parece que se acerca la fecha

barrio jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea pues como le decía en la última ocasión señor barrio se ha ido
trabajando en cada uno de los extremos que después si tengo tiempo

se han ido acercando posturas y uno de los elementos principales en el primer pilar en el que estábamos trabajando todas las comunidades de la cornisa era el tema de los ecoesquemas que confiábamos recuerda usted que le dije que confiábamos que aquellos acuerdos verbales se plasmaran después en documentación

queda un tema en pagos redistributivos para acordar los tramos correspondientes pero prácticamente podíamos dar por cerrado

y en este momento se está finalizando o avanzado bastante en el trabajo sobre el segundo hoy precisamente era el último día para enviar alguna de las modificaciones sugerencias aportaciones que teníamos desde las comunidades autónomas

primera quincena podamos ya también tener cerrado el segundo pilar para que pase a exposición pública

en la unión europea eskerrik asko tapia andrea barrio jauna

que continuase en el siguiente turno porque yo creo que hay elementos importantes y

el segundo pilar el de desarrollo rural tenemos sobre la mesa

con esa cuestión y sí que me gustaría saber qué son los acuerdos alcanzados en esta materia porque es ciertamente importante y en eso sí que vemos que está todavía más encallado que otras cuestiones bueno se han dado por cerrado los ecoesquemas

por resolver está el tema de las regiones agronómicas ese tema está cerrado está el tema de las regiones agroecológicas

ese tema está cerrado y después una de las cuestiones que ha salido sobre

la consulta la exposición pública que se va a hacer qué calendario de

y quienes van a participar o quienes estos son los llamados a participar en esa consulta y sobre qué documento cuándo va a estar ese documento definitivamente hecho y no sé qué procedimiento van a tener lo van a votar

hay algún procedimiento porque hay una cuestión que usted me gustaría que me comentase que es el contacto que haya tenido usted con las organizaciones profesionales del sector las organizaciones profesionales vascas agrícolas ganaderas del sector rural no sé qué percibe usted porque nosotros percibimos

es verdad que es distinto las comunidades autónomas y las regiones y el que el concepto agrícola y ganadero en españa pero en cualquier caso también hay una gran inquietud en las organizaciones profesionales vascas lo vemos lo vemos en sus publicaciones lo vemos en sus contactos

saber cómo palpita el corazón del sector muchas gracias eskerrik asko barrio jauna tapia andrea zurea da hitza

a todas las cosas que me ha preguntado creo que no me va a dar tiempo bueno en relación al primer pilar le decía que estaba todo cerrado si bien hubo un debate intenso sobre temas de regiones agronómicas

en ese caso nuestros agricultores y agricultoras sí están preocupados hubieran querido

por cerrado y acordado a pesar de que hubo un intenso debate en la pasada conferencia sectorial

sí señalar que tenemos tres aspectos concretos sobre los que nos gustaría incidir en primer lugar la propuesta de asignación de fondos feader

podemos se nos pueden asignar muchos más en este momento se consideran aproximadamente unos ochenta y dos millónes podemos acceder a ciento veinte millónes entendemos porque tenemos capacidad

con el volumen que tenemos de actuaciones y de ejecución podemos acceder a más ese es un punto de debate intenso con el ministerio en materia de incorporación

de jefe de explotación para aquellos jóvenes que también puedan estar trabajando en formas jurídicas como cooperativas que no se había considerado y tenemos

desde luego trabajado y finalmente que el sistema de control de ayudas dado que existe el principio de subsidiariedad y de lo que llaman en europa el new delivery model

autónomas de que ese mecanismo se pueda llevar desde las propias comunidades autónomas son esos tres los puntos principales en los que estamos trabajando desde euskadi pero también tengo que decirle que está bastante adelantado el trabajo con todo el sector

cuáles son la situación de las negociaciones y dónde se pueden encontrar los principales problemas

que tampoco han quedado excesivamente son dañinos para nuestro sector por ejemplo en las regiones agronómicas

entendemos que el ministerio también tiene que atender al conjunto del estado y el que exista una zona especial para la zona de regadío en álava pues también la considerábamos positiva por tanto bueno yo creo que ha quedado bien el primer pilar dentro

buenos días señora consejera el programa de recuperación y resiliencia

en su primera edición de diciembre de dos mil veinte no recogía ningún proyecto relativo al sector aeronáutico pese a ser uno de los grandes perjudicados por la crisis del covid es un tema que hemos hablado en este foro durante

a pesar de que tenía una manifiesta falta de detalle y de concreción pero vimos que había cuatro proyectos que habían sido incluidos dentro del estatal relativo a la industria aeroespacial y eso nos

sin embargo la semana pasada volvimos a la depresión al constatar a través del dossier de prensa del consejo de gobierno del diecinueve de octubre

para la selección de los proyectos se volvían a excluir los proyectos del sector aeronáutico volviendo a la situación de partida por ello hoy me veo en la obligación de nuevo señora consejera de preguntarle

ha sido seleccionado dentro de los tres que han remitido al gobierno de españa

aeronáutico vasco de las ayudas de los fondos next siendo uno de los más perjudicados por las crisis

tapia andrea gil jauna supongo que siguen ahí pero no aparecen entre los tres que han

pero usted sabe cómo está este sector hemos dicho que es uno de los más afectados por la crisis del covid

pero es que sin haber superado esta crisis la crisis del covid diecinueve el sector está siendo atacado digamos por una segunda importante crisis la crisis de las materias primas que están reduciendo sus márgenes comerciales y ahondando las pérdidas que todavía arrastraban por el covid hemeretzi está sufriendo este sector crisis sobre crisis

solos y diría que abandonados por el gobierno vasco que ni está ni se le espera

yo esperaba que usted me hablase del aerofondo que efectivamente podría ser una solución

su gobierno lo que ha mostrado en este tema es una importante falta de implicación lo décimos porque en mayo en una reunión entre el ministerio de industria y la consejería que usted dirige supimos que el gobierno vasco se planteaba coinvertir con el fondo pero desde entonces

también hemos visto cómo el gobierno vasco se lavó las manos en el conflicto laboral

todavía hay trabajadores en su casa a la espera de una solución y esta misma actitud que es una constante esta misma falta de implicación la vemos en las insuficientes ayudas del programa hazitek que en el módulo de competitivos del dos mil veinte solo dio en uno coma dos por ciento de los fondos a empresas asociadas a hegan y en el de estrategia en el de estratégicos las ayudas aeronáuticas no superaron el quince por ciento de los fondos

que la única pretensión del gobierno vasco no es el mantenimiento de los proyectos industriales sino asegurar su cupo en el consejo de administración la situación de las ayudas elkartek es aún peor para el sector aeronáutico ya que en dos mil veinte de los treinta y ocho millónes de presupuesto del programa solamente uno

respuesta parlamentaria y ahora nos encontramos con la mala noticia repito

esto pero más allá de las palabras señora consejera los hechos demuestran bien a las claras cuál es su actitud respecto a este tema gracias eskerrik asko

señor gil ha pretendido usted hacer un totum revolutum con el sector aeronáutico y de verdad es que nadie se cree

está haciendo a ver vamos a ser un poco claros primero y principal

en primer lugar esos fondos llegan a través de diversos mecanismos ayudas territorializadas para una serie de actuaciones que se consideran en las conferencias sectoriales dos

bastante habituales o que vienen a sumarse a aspectos habituales a los cuales acude cualquier empresa en concurrencia competitiva tres

del automóvil automoción vehículo eléctrico y conectado que todavía por cierto no ha salido a convocatoria pública no hay ninguno más y cuarto

de los cuales dimos cuenta de cuáles habían sido elegidos más que proyectos áreas importantes que por una parte se acogían o estaban acordes a lo que pretendía europa con los fondos next a lo que pretende y en segundo lugar además está acorde con las transiciones

en segundo lugar el sector ha sufrido una crisis y dice que ha tenido menos ayudas por qué ha tenido menos ayudas cuáles son

por tanto tiene las mismas oportunidades que cualquier otro sector los problemas de energía de materiales

de cualquier tipo de componentes son exactamente iguales en el sector aeronáutico que en cualquier otro sector por tanto no es que está especialmente dañado está exactamente igual que cualquier otro tipo de sector

hazitek elkartek concurrencia competitiva cuanto mejores son los proyectos más fondos reciben y no van

que son adecuados que se califican bien y que tienen capacidad de desarrollarse son financiados en este sector y en cualquier otro

no van por sectores van en concurrencia competitiva como usted bien sabe aerofondo en esa reunión estaba presente el representante del gobierno vasco evidentemente el gobierno

y es en la que por parte del ministerio se nos transmite no hace falta

ahora bien se ha vuelto a abrir una segunda fase en la que hemos vuelto a poner a disposición nuestros recursos y parece que vamos a poder participar veremos si se traslada a la realidad pero no vamos a modificar ninguna postura respecto al sector aeronáutico porque creemos que estamos cerca y porque lo estamos trabajando

el que de esos tres proyectos que se enviaran a la ministra calviño no estén presentes más de mil y pico proyectos que están en

muchas convocatorias y muchas formas de trabajar para que se puedan llevar a la realidad

bat egiten zutela neurri batzuetan behintzat adibidez se aprobará un código de conducta en el que se recogerán junto con las obligaciones éticas los valores que informan los procesos selectivos y los derechos y obligaciones como miembros de los tribunales así como las normas de obligado cumplimiento los miembros de los tribunales firmarán asimismo un compromiso ético hori zen era una de las medidas

en la página setenta y uno dice la redacción de estas obligaciones y normas de conducta será encargada el ivap dice también la aplicación de esta medida tiene carácter

sobre la formación de los miembros de los tribunales medida recogida por todos y especifica que será organizada y dirigido perdón organizado y dirigido por el ivap medida veinticinco encomendar al ivap la elaboración de las pruebas teóricas

esta medida también tiene carácter de aplicación inmediata o la medida veinte sobre la profesionalización y especialización de los miembros de los tribunales en dicha medida se recogían diferentes concreciones a aplicar puedo seguir denunciando diferentes medidas pero bueno no tengo tanto

pero se establecían diferentes medidas con carácter de aplicación inmediata eta neurri guztiak orain alboan geratuko dira la cuestión es

no se van a cumplir los compromisos adquiridos de carácter inmediato por parte de osakidetza

al ivap o quizás ha sido el ivap el que ha renunciado a participar por qué porque se ha sentido utilizado

porque no se le dio en su día el tiempo suficiente para preparar los exámenes y ahora tampoco se le quiere dar tiempo para ello hay que recordar que se trajo en su día consigo que el listado de las y los profesionales que deberían de preparar los exámenes

hemos cumplido con los compromisos adquiridos hace dos años por el departamento de salud ante el parlamento para dar cuenta del nuevo modelo de los procesos selectivos

de que se respetará su derecho a la igualdad de oportunidades aquel nuevo modelo tal y como explicaba la anterior consejera de salud

ni el del departamento de salud es el modelo fruto de la colaboración entre diferentes agentes

aportaciones como la que usted ha mencionado del profesor jiménez asensio que conocieron en la comisión de salud

aportaciones de agentes políticos sindicales de colegios de medicina

los compromisos concretos en relación con los tribunales son la reducción del número de integrantes que la composición de los tribunales elija por sorteo la aprobación de un código de conducta que recoja obligaciones éticas así como los derechos y obligaciones de sus integrantes y la incorporación de un programa de formación para las personas que forman parte de los tribunales

más personas puedan entrar en ese sorteo en concreto se ha reducido a tres años el número de años que es necesario tener plaza en propiedad para ser integrante de los tribunales y los compromisos más importantes en relación a los exámenes para garantizar la transparencia del proceso

dotar a quienes formen parte de los tribunales de un manual operativo para la elaboración y corrección de las pruebas ya se está trabajando en su elaboración

esa era nuestra intención así lo trasladamos pero el ivap nos ha trasladado la imposibilidad técnica de acometer esa tarea luego no hemos dejado

de elaborar los exámenes pero seguirá participando en los tribunales y contribuyendo al adecuado desarrollo del proceso con todas las garantías

la responsabilidad de la elaboración de las pruebas o si encaja esa tarea a una instancia externa con experiencia y conocimiento en esa materia este hecho

de convocar una oferta de empleo con total transparencia y las máximas garantías para las y los

no podemos olvidar las definiciones y las indicaciones que se realizaron aportaciones y estudios que tanto usted como yo algunos

que indicaban cuál debe ser la tarea de los tribunales

con el objetivo de evitar que una única persona sea conocedora del contenido final

pruebas con el fin de asegurar que nadie que participe en el proceso de selección pueda tener conocimiento del contenido final de la prueba

los tribunales son soberanos en la realización de las pruebas tienen que

son órganos exclusivamente técnicos y gozan de autonomía funcional para garantizar la objetividad de su actuación deben ajustarse

mérito capacidad publicidad objetividad y celeridad son deberes fundamentales la obligación de respetar la objetividad neutralidad imparcialidad en el procedimiento selectivo

que ya están trasladadas a la parte sindical obedecen a esos objetivos y son concretas

sin ponerlos en cuestión o bajo sospecha antes de que se inicie el mismo y sobre todo espero que no vuelvan a elevar a esas sospechas a otros responsables públicos de osakidetza o del departamento de salud hay medidas concretas

y que se están todavía además negociando no lo olvidemos y no pongamos el problema en

y se ve que otro tipo de informaciones como la relativa a los motivos del ivap nosotros hemos trasladado al ivap el compromiso que adoptamos

nos ha respondido diciendo que técnicamente no puede llevar a cabo las pruebas selectivas los exámenes la elaboración de los exámenes pero que va a seguir participando en el resto del proceso como hace con otras administraciones

que pueda revisar cuáles son los procesos que lleva a cabo y verá que su participación no es necesariamente la elaboración de los exámenes por eso no solo no dejamos al ivap cosa que no hemos hecho en ningún momento sino que además

a garantizar esa transparencia esa corrección de las pruebas

participando no solo ya lo sé yo que no solo es eso pero también es eso y ahí está por eso

no voy a recordar que el tiempo y la justicia además han terminado por dar la razón a los anteriores responsables del departamento y de osakidetza sobre quienes se extendió una injusta sospecha respecto a su responsabilidad en la alteración del proceso opositor ha quedado claro

la no responsabilidad de los máximos rectores de entonces en sucesos que aún están siendo objeto de investigación judicial entonces y ahora

las bases de un proceso que ofrezca las mayores garantías a todos y todas las aspirantes que quieran entrar a trabajar seguiremos trabajando en ello y seguiremos trabajando para que antes que tarde

esas convocatorias que ayuden y contribuyan

es tan necesaria en todas nuestras instituciones eskerrik asko eskerrik asko sailburu andrea

y para cuando se hacía efectiva la retirada del menú muchos alumnos y alumnas ya habían terminado de comer hubo varias intoxicaciones leves ninguna grave pero este episodio deja preocupadas a las familias

desde mil novecientos noventa y cuatro y le voy a avanzar brevemente algunas cifras en el presente curso académico comen diariamente en nuestros centros educativos en torno a

a través de las empresas de catering se proporcionan en torno a treinta y tres mil de dichos menús diariamente

lotuz en nuestro caso colaboramos con cuatro empresas que dan trabajo

y que nos permiten satisfacer adecuadamente las necesidades nutricionales

eskerrik asko es verdad lo que usted ha dicho es lo que llevamos oyendo veinte años a diferentes responsables de personas que gestionan los comedores escolares que el sistema es fiable que es seguro que cumple con todos los requisitos de seguridad alimentaria y puede ser verdad además bueno lo que pasó la semana pasada una intoxicación

en cualquier sitio pero da la casualidad ez da gertatu sukalde propioak

miles de menús al día en cocinas centralizadas con productos de procedencia kilométrica con platos preparados muchas horas antes almacenados transportados que se sirven en unas condiciones de estrés y ruido y precariedad laboral que se higiene sin más explicación que la de que pase el siguiente turno

ni con el proyecto educativo ni siquiera con lo local porque los comedores escolares son para el gobierno vasco un mero servicio complementario como usted ha dicho una mercancía más

cada año se reparten más de dieciséis millónes de menús en los comedores de nuestros centros públicos todos ellos gestionados por cuatro empresas de catering y esto porque la normativa actual solo contempla que se puede hacer ese modelo el de gestión directa el gestionado por empresas de catering

ni compra de productos de cercanía para los centros públicos pero sí para los concertados aunque sea la misma empresa y entre un centro y otro medien unos escasos metros por cosas como esta muchas familias que apostamos por la escuela pública nos preguntamos baina zer jaten dute gure seme alabek zer onartzen ditu zergatik

ezberdintasun horiek eta hor sortzen dira susmoak porque todas recordamos la multa de los dieciocho millónes que les pusieron a las empresas de catering acusándoles de fraude

en las últimas adjudicaciones se ha bajado el precio un diez por ciento pero eso no ha repercutido en las familias ha repercutido en la calidad de los productos que se utilizan y también se recuerda aquí la moción de dos mil diecinueve cada día estamos más incrédulas con sus compromisos

con este nuevo escenario que han abierto por favor espero dezagun ikastetxe publikoetan behar hori

la prestación del servicio de comedor se realiza de acuerdo a los más rigurosos estándares de calidad y seguridad alimentaria establecidos en la normativa vigente osasun sailak egindako

eraginkorra dela horrelako egoeretan jokatzeari begira de acuerdo con las conclusiones que arroje el correspondiente informe de investigación alimentaria

ante un servicio tan sensible como la alimentación en centros escolares

sailburuak osasun sailburua tras unas semanas en las que

en euskadi hemos visto con preocupación cómo están aumentando los números del contagio parece ser que

y nos preocupan los datos sobre todo comparativamente en relación a otras comunidades autónomas están creciendo mucho más

en un ochenta y uno coma veinticuatro mientras en el resto de españa se sitúa en un cuarenta y seis por ciento parece ser que puntos por encima los crecimientos

y la presión hospitalaria también podemos decir que si no se ha notado en las uci

se note los ingresos en planta se han duplicado en dos semanas por eso señora consejera le preguntamos concretamente ante estos datos qué valoración

de la situación epidemiológica con un aumento de los contagios en euskadi por encima de la media nacional eskerrik asko garrido andrea sagardui andrea zurea da

yo creo que aun no es yo no lo sé al menos si se puede hablar de sexta ola

se debe de hablar estamos en un momento en el que la evolución va a determinar y también las medidas que vigentes cumplamos va a determinar cuál va a ser el desarrollo de la misma y ojalá tenga razón y no estemos ante una

ha sido creciente de forma moderada pero creciente y que eso ha tenido en indicadores como puede ser la hospitalización pero analizar esta situación en términos comparativos con otras comunidades autónomas y con la media de las mismas no tiene mucho sentido perdóneme y eso lo hemos comentado en más ocasiones además

los mismos patrones de crecimiento y decrecimiento con diferencia de semanas o como mucho de días en su evolución

con respecto a la media lo conoce también y por ello hemos mantenido ligeramente por encima durante esos meses nuestros indicadores pero la verdad es que la incidencia creciente en euskadi como en otras comunidades se mantiene dentro de unos parámetros bajos

con números de casos tan reducidos cualquier

tiene gran incidencia sobre los porcentajes por eso ante esta situación nos mantenemos

diario que pueda ocurrir y por el momento no se ha considerado la adopción de nuevas medidas de prevención estamos haciendo test y cribados allí donde la aparición posible o la confirmación de brotes así lo requieren según nuestros expertos en salud pública y en epidemiología siempre siguiendo criterios técnicos

pero mientras la tendencia siga siendo creciente mantendremos esa estrecha vigilancia de su evaluación eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea garrido andrea zurea da hitza por una parte me gustaría aclarar que para nada

la señora consejera lo ha señalado lo dirán la evolución epidemiológica y los datos y esperemos

estamos en un escenario de repuntes de aumento de los contagios y los hechos la evidencia nos dicen que muy por encima de la media nacional y de otras comunidades autónomas esta vez aquí no ha llegado el virus más tarde ha llegado más pronto porque otras comunidades autónomas tienen unas cifras

que se hacen más pruebas porque según los datos del ministerio de sanidad

realizan están realizando más pruebas asturias baleares canarias cantabria

y la rioja y navarra euskadi una media de mil cincuenta y seis coma setenta y dos

el tema de las pruebas no se puede esgrimir como argumento justificativo mire le hacía esta pregunta sobre todo porque también su viceconsejero tuvo ocasión de hablar sobre este tema

rigurosamente las medidas de prevención pero hablaba de un control

verificar que se cumplen las medidas de prevención de aparente normalidad creo que efectivamente los datos no se pueden mirar en un momento puntual señora consejera

esta pandemia y la evolución qué casualidad más restricciones las restricciones más altas más contagios cuando ya salimos de la emergencia sanitaria

por qué en euskadi siempre estamos a la cabeza de contagios que creo que no es una buena noticia

las medidas que correspondan de acuerdo a la evolución pero lo que yo quiero decir es que y mi grupo lo que quiere poner de manifiesto es que habrá que hacer un análisis de qué está pasando porque sin duda este virus está golpeando

eso está clarísimo están ahí los datos y yo creo

un análisis y por parte de su departamento y desde la responsabilidad que ostenta

entiendo señora garrido que la última afirmación ha sido una forma de hablar ahora porque como usted entenderá y creo que ya sabe en ningún momento hemos dejado desde el departamento de salud ni de estar preocupados por la evolución de la pandemia ni hacer el seguimiento diario de la pandemia por parte de todas nuestras entidades yo le diría que esa afirmación que hace usted de que está muy por encima le invitaría

los momentos de inicio de la pandemia y cuáles son los valores para que vea y probablemente se encontrará con que el ascenso en este momento este momento de ascenso

del incremento en euskadi no es más alta que en otras comunidades desde que el proceso de vacunación alcanzó los niveles que actualmente tenemos en euskadi prácticamente el noventa por ciento de la población diana con la pauta completa que tomamos como indicador también

ustedes lo saben incluso solicitaban que se actuara sobre la tabla de indicadores antes de levantar la emergencia sanitaria nosotros hemos adecuado

vacunada que no encontrarlo yo le diría que

la media del estado es del cuatro coma cuatro solo presentan mejores datos galicia ceuta y cataluña a los que

voy a ser muy breve en rusia en reino unido en otros países europeos se empiezan a aplicar ya restricciones

ajeno nosotros estamos viendo esto como algo que vemos ya muy cercano y tememos que ocurra lo mismo en nuestro país hasta ahora

y aquí mismo estamos viviendo un empeoramiento de la situación con más fallecimientos y más hospitalizaciones hasta ahora ha sido un poco la imprevisión de los gestores

ha facilitado su expansión como con consecuencias además muy dramáticas por todos ya conocidas aunque las cifras exactas de fallecidos sigan siendo aún una incógnita a la improvisación se suman las decisiones judiciales la última relativa al segundo estado de alarma

en el congreso español por su partido por el pnv inconstitucionalidad que pone en tela de juicio la ley antipandemia esta ley antipandemia vasca que se ha aprobado en este parlamento

en concreto plantea serias dudas a cuestiones fundamentales de esa norma como son la capacidad de limitar los movimientos

todo ello amparado en el estado de alarma como digo inconstitucional en consecuencia sería interesante que explicase hoy en esta cámara cómo afecta esta circunstancia al momento de cierta incertidumbre que ahora estamos viviendo

tenemos entendido que están discutiendo con el gobierno de españa estas cuestiones algo que vox tiene claro y que ya ha recurrido repito ante el tribunal en cuestión

nos preocupan mucho a nosotros y a muchas personas de la ciudadanía hasta qué punto es preocupante la evolución actual de la pandemia

viceconsejero de salud por el señor quintas acerca de unas fiestas navideñas seminormales cómo está afrontando la consejería de salud y el labi la nueva situación que se plantea hasta qué punto es una amenaza la variante delta plus del virus y una última pregunta aún cree que la ley antipandemia vasca es una herramienta útil para gestionar y luchar contra la pandemia que previamente o que estamos viendo que va a llegarnos y ya para terminar lo que quiero decir es que ojalá quede todo en un susto más que ojalá la situación siga bajo control

tanto de las libertades como también de la confianza eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea erantzuteko sagardui andrea zurea da hitza

nos van realizando desde el inicio de la legislatura creo que solo hay una respuesta que a usted le gustaría escuchar y es que

ya siento no le voy a dar esa satisfacción porque hemos hecho estamos haciendo y seguiremos haciendo

durante la pandemia siempre se ha decantado por quienes ponían en duda las evidencias científicas sobre las vías de contagio de la covid diecinueve

ha abanderado todas las peticiones fuera cual fuera el sector económico social del que provenían que exigían la eliminación de medidas preventivas

y su impacto negativo en la salud y economía de esta región por favor

sí si yo le dijera que no vamos a hacer nada lo que le digo es que como hemos hecho durante estos meses seguiremos atentos a la evolución de la pandemia por si fuera necesario adoptar medidas preventivas superiores a las que tenemos en estos momentos porque

que las tenemos y por cierto la cifra de fallecidos en euskadi no es ninguna incógnita toda la población la conoce entiendo por lo tanto que usted también

lo que le estamos preguntando es qué medidas van a adoptar nos gusten a nosotros o no queremos saber información es lo que buscamos también

gobierno es algo que dijo el señor quintas seminormalidad yo creo que todos estamos en el derecho de saber qué es esa definición para ustedes y saber a qué nos podemos tener de aquí a

y de valorar todas las aportaciones que en forma de crítica o de propuesta

sí como suelen ser en ocasiones las suyas o no son concordantes con lo que se propone desde el gobierno

que la incidencia es mayor en la población más vulnerable que es la de menos de doce años por no estar vacunada

científicamente probado por mucho que usted no quiera en contra de los criterios científicos de las asociaciones de los investigadores pero no usted siempre en la contra y tenemos encima de la mesa

uno de los grupos más vulnerables en estos momentos por otro comunidades autónomas como

en esos colectivos o por lo menos lo apoyan en este contexto solo podemos hacer una cosa es nosotros seguir con las circunstancias en euskadi poniendo en valor y aplicando la experiencia y los instrumentos de los que disponemos para frenar al avance del virus y atender lo mejor posible a las personas que lamentablemente necesiten asistencia sanitaria o ingreso hospitalario por cierto se lo he contado en más de una ocasión

con la población en el número de hospitalizaciones y en el número de las personas fallecidas datos que en euskadi siguen siendo mejores que la media

dice entre otras cosas que solo un quince por ciento de la población piensa que podría haber una sexta ola pero que la sociedad avala las medidas del gobierno

la valoración del gobierno vasco en un seis coma tres ha subido y el uso de la mascarilla abogan por mantenerlo ocho de cada diez personas consultadas para los próximos meses en conclusión respecto a otras encuestas se mejora la percepción de que en euskadi lo hemos hecho mejor que en otras comunidades autónomas y lo dice la ciudadanía

para poner en marcha esta experiencia piloto en euskadi sabemos

compleja porque es necesaria la colaboración de diferentes sistemas y en ello venimos ya como le decía trabajando con el asesoramiento de

piloto en el territorio histórico de álava que además

compromiso ochenta y tres que el gobierno tiene en materia de protección de menores parte hartzen duten operadore guztiekin lan handia egin da

porque el modelo barnahus no es igual para islandia para estados unidos o

sí que estamos trabajando lo vamos a seguir haciendo presentaremos en las próximas jornadas técnicas el informe que save the children ha realizado para la implantación con garantías del modelo en euskadi

y como no podía ser de otra forma se ha tenido en cuenta las aportaciones que ya se trasladaron en la ponencia parlamentaria que la legislatura pasada estuvo trabajando en esta cuestión sin más puedo asegurarle o por lo menos lo vamos a intentar que en este pilotaje vamos a contar con todas las experiencias con todo el trabajo tanto

de las instituciones y de los departamentos implicados para que podamos asumirlo con garantías

etxebarrieta por su mano tendida yo siempre creo que

creo que la protección la prevención y la promoción de la infancia y la adolescencia es algo en lo que coincidimos plenamente sí lo que le quiero recordar es que en esa ponencia que ya desde la legislatura pasada se vino trabajando

se hicieron una serie de conclusiones y además se hicieron una serie de afirmaciones que vienen a corroborar la necesidad de que se ponga en marcha este modelo lo hemos hecho no desde únicamente el conocimiento interno que el departamento podía tener sino con el conjunto de los agentes que están implicados en esta cuestión hemos recibido estas iniciativas y estas reflexiones con mucho interés nosotros

entendemos que es algo necesario de implementar en euskadi esa fue una de las principales iniciativas y conclusiones que emanaron de estas ponencias y además le tengo que recordar que trabajaron

reconocidos como el ararteko como responsables de investigación de las policías municipales como la oficina de atención a las víctimas

numerosas instituciones que deciden y que expresan su voluntad de trabajar de una forma conjunta para poder dar

de abordar lo que queremos es aglutinar en un único espacio

sea el más detallado y completo que no revictimicemos a las víctimas y que en esa

esperemos poder seguir abordando y mejorando nuestros eskerrik asko

habéis escuchado al consejero doscientos mil euros de ayudas eta eurek no no no

no no es una equivocación son dos millónes transkripziora

no no puede ser pero es eta nire galdera da kopuruaren

toki itxietarako tres uso de la mascarilla se reforzará la vigilancia del cumplimiento de la obligatoriedad del uso de mascarilla

se debe reforzar la transmisión de este mensaje a los potenciales asistentes

no se permitirá ni la venta ni el consumo de alimentos y bebidas durante estos eventos hau da osasun arloak dioena hemen eta han

presidenta buenos días señorías señores consejeros señoras consejeras parece que el tema del tav

y yo no sé si a ustedes les pasará lo mismo que a mí como vasca me siento avergonzada de llevar treinta años debatiendo

para cuando llegue de verdad que se habrá inventado la movilidad en vehículo sin rozamiento propulsados

del transporte y al paso que vamos señor arriola

en los meses venideros lo que sí quiero es y compartirá usted conmigo quiero que llegue el tav para situar a euskadi a la altura que se merece y mire señor arriola de verdad no es que a mí personalmente

pero estará de acuerdo conmigo que no se puede gestionar peor por parte de los diferentes gobiernos que han tenido entre manos la alta velocidad en el país vasco bueno algunos pero el último año

no hay nada peor que generar incertidumbre en la población con respecto a cualquier proyecto

pues se desacreditan a sí mismos quienes gestionan y mire le voy a hacer un pequeño resumen

la primera el tav no llegará hasta dos mil veintiséis la segunda dos mil veintisiete la tercera que llegará pero que puede que sin soterrar porque así llegará antes no sé si llegará antes pero bueno luego

fuera de bilbao y de vitoria no sabemos la penúltima que soterrado

en el que se tienen que poner fechas y dinero para la llegada del tav ahora sí

y menos mal de verdad que el último episodio de esta larga telenovela que lleva en antena treinta años nos da la razón a quienes creemos que el tav tiene que llegar

porque es importante que llegue claro pero también es importante

y así eliminar aquellas horribles brechas ferroviarias que a lo largo del siglo pasado dividieron la mayor parte de nuestras ciudades y

que con lo rápido que evolucionan en transporte por vía férrea el resto de países europeos nosotros los españoles llevamos un pues cuantísimos años de retraso

de esta nuestra tierra contaminan mucho más y la alta velocidad es una oportunidad para disminuir

los países desarrollados pero no solo eso sino que también es importante la llegada del tav económicamente

porque estamos en una ubicación geográfica estratégica para unir europa

le pedimos coordinación con el gobierno de españa para que aborde además de los tramos necesarios para que el país vasco sea competitivo con el resto de europa que el tav llegue con su enlace

ya realizado y mire en el mundo moderno en el que vivimos

sea el futuro y no se dejen dominar por quienes se asustan de cualquier evolución social aquellos para los que cualquier tiempo pasado fue mejor que el presente están equivocados los vascos quieren modernización a poder ser sostenible y qué más sostenible que eliminar los coches y los camiones de nuestras carreteras porque con el tav estaremos todos conectados en un abrir y cerrar de ojos no dilaten más en el tiempo la llegada de la alta velocidad

cuanto antes señor arriola yo le preguntaba le interpelaba cómo se propone su departamento que llegue definitivamente
el tav al país vasco y con qué calendario gracias eskerrik asko

gracias señora presidenta señora larrea desde el mismo momento en que hace poco más de un año asumí de nuevo la responsabilidad en materia de transportes me puse a trabajar para impulsar la llegada del tren de alta velocidad a euskadi

en las obras ejecutadas por nuestro departamento en el ramal guipuzcoano obras que como sabe estamos llevando a cabo mediante encomienda de gestión

que es el titular de la infraestructura y por otra parte también a través de fórmulas de cooperación interinstitucional que favorezcan la ejecución de la línea de alta velocidad en el resto del territorio ya en mi primera comparecencia de esta legislatura dije entre otras cuestiones

del tren de alta velocidad y poder concretar unos plazos realistas de ejecución de la infraestructura

coyuntura económica y eso es lo que hice en marzo del pasado año trasladé el horizonte que maneja el gobierno para la finalización de los trabajos de la y vasca

como ya conoce a finales de dos mil veintiséis y principios del año dos mil veintisiete y también dije que en este horizonte de finalización no se encontraban las integraciones urbanas en bilbao y vitoria gasteiz porque ambas están en estudio informativo y a ellas me referiré más adelante

he comparecido en este parlamento en no menos de cinco ocasiones

y lo seguiré haciendo en tantas ocasiones como sea menester porque ciertamente estamos hablando

esencial para conectar los tres territorios vascos con el resto de españa y europa y para poner en valor la posición estratégica de euskadi en el corredor atlántico una infraestructura que

tanto de pasajeros como de mercancías fortalecerá el desarrollo de euskadi y su competitividad yo entiendo que la

de la infraestructura y su envergadura le pueda generar a usted cierta confusión

las dudas que se plantean pero una cosa es no entender la complejidad del asunto y otra es hacer calificaciones como hace usted en su escrito

de comparecencia en esta cámara personas del estilo de tejemanejes

el servicio o en el momento que ello sea posible y eso se llama interés general señora larrea

lo que hay es un trabajo riguroso en colaboración con el resto de instituciones para avanzar y hacerlo además de la posible nuestro compromiso con el desarrollo del tren de alta velocidad en euskadi es total el origen de la intervención del gobierno vasco en la ejecución de la y griega vasca mediante distintas encomiendas de gestión

de esta gran infraestructura en el ramal guipuzcoano desde bergara a astigarraga que está ejecutando nuestro departamento están terminados todos los tramos a excepción del hernani astigarraga y los correspondientes a la estación de

que se encuentran en distintas fases de ejecución la situación actual de los tres tramos es la siguiente hernani y astigarraga cuentan con un presupuesto de cuarenta y seis millónes y está ejecutado ya al cuarenta y dos por ciento

tiene un presupuesto una inversión de ochenta millónes de euros y comenzó en julio del veinte

también está en ejecución el setenta y cuatro por ciento del total del trazado guipuzcoano que consta de cincuenta y nueve kilómetros de longitud discurre soterrado mientras que un catorce por ciento va sobre el viaducto y un once por ciento restante

va a contar con treinta y cuatro túneles y treinta y dos viaductos por su parte los ramales de la y griega vasca

como usted sabe están siendo ejecutados directamente por adif en la actualidad

ocho se encuentran en distintas fases de ejecución y uno está ya adjudicado el último por lo que en breve comenzarán las obras la previsión es que la plataforma ferroviaria de la práctica totalidad de estos tramos

y que posteriormente se complete con el resto de instalaciones

etcétera hasta aquí las actuaciones que las administraciones competentes en materia estamos ejecutando en euskadi

y este es el caso de los accesos a las ciudades de vitoria gasteiz y bilbao con sus respectivas estaciones en fase de tramitación ambiental una fase larga

correspondientes al estudio informativo del nudo de arkaute y la integración soterrada en vitoria

y las plataformas ciudadanas el ambiental es un trámite que evidentemente no se puede obviar y determina los procedimientos posteriores aun así

y fruto de este trabajo es el protocolo que esta misma semana hemos aprobado en el consejo de gobierno y que entre otras cuestiones habilita al ministerio de transportes movilidad y agenda urbana al citar

el proyecto básico el soterramiento de vitoria gasteiz que posteriormente y una vez aprobado el estudio informativo se concretará en los proyectos constructivos

esta decisión consensuada por parte de todas las administraciones que conforman la sociedad

es algo inusual pero nos permitirá acelerar el ritmo de tramitación

nuestro propósito es avanzar también en bilbao y para ello es necesario y así lo he hecho saber a todas las partes que se firme cuanto antes el protocolo en el que se plasmen los compromisos

de las instituciones que van a participar en este proyecto y tratándose como se trata de una infraestructura de país sería conveniente que contara con el mayor apoyo posible

las instituciones este protocolo es además un paso previo e ineludible para

en bilbao por otra parte

que el soterramiento ferroviario del tren de alta velocidad en bilbao y vitoria gasteiz no se ha cuestionado

y que todas las instituciones implicadas tanto el gobierno de españa como el gobierno vasco como los ayuntamientos de bilbao y vitoria y las diputaciones al menos la de álava trabajamos para que sea una realidad

junto a ello también he mostrado mi interés como consejero de transportes por el hecho de que el servicio entre en funcionamiento en el momento que pueda hacerlo buscando fórmulas de forma consensuada con todas las administraciones

la puesta en marcha del tren de alta velocidad y su uso por parte de la ciudadanía vasca

de las obras de soterramiento en las dos ciudades sin que esto suponga ni poner en cuestión los soterramientos ni aparcarnos

el compromiso del gobierno vasco con el tren de alta velocidad señora larrea es total

pasos para que llegue a euskadi en la forma acordada por todas las administraciones es decir a través de las integraciones soterradas de vitoria y bilbao en superficie

y trabajando para que sea una realidad lo antes posible

me sabe mal tener que contestarle esto que le voy a decir usted de verdad ha asegurado que va a acortar plazos he podido escuchar eso

usted acaba de decir que no se ha cuestionado el soterramiento de las estaciones de vitoria y de bilbao pero vamos a ver cuando ustedes hablan

claro es que no se ha cuestionado claro dan otra solución un plan b y de verdad me suenan todo a excusas y no le sepa mal lo que le estoy diciendo pero es que no se trata de que usted me explique a mí

son ellos porque creo que su departamento no se ha expresado bien hecho llegar una certeza a la población para que realmente tengan certezas y se trata de esto de llegar a certezas y yo

van argumentando lo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia de los treinta años del tav bueno usted ha argumentado el último año pero es que

no sucedería de esta manera a cualquier empresa que le digan que tarda treinta años en hacer

que soy conocedora de las dificultades que puede llevar a cabo una infraestructura de esta envergadura vale o sea lo tengo clarísimo y soy la primera pero sí que es cierto que yo creo que ustedes se tendrían

que poner delante del espejo y saber cómo explican las cosas a la ciudadanía porque la ciudadanía no lo está entendiendo y mire le voy a decir una cosa el partido nacionalista vasco el partido que apoya este gobierno su partido también apoya este gobierno

al gobierno de sánchez y a sus mentiras les pasa como al resto de españoles y señora arriola usted echa balones fuera anuncia planes b anuncias que sí que no que yo no pongo en cuestionamiento el soterramiento que sí lo pongo

que ha ezkio que a vitoria que vamos a ver la realidad es la que es y es incuestionable retrasos retrasos y retrasos

creo que en mi primera intervención ha quedado muy claro el compromiso de todo el gobierno vasco y el mío propio como consejero de planificación territorial vivienda y transportes

y con la llegada de la alta velocidad a euskadi tanto es así que hemos avanzado ya desde hace tiempo

el que finalmente resulte en las integraciones en las ciudades de hecho la integración soterrada

de las instituciones implicadas en el desarrollo de esta infraestructura gobierno vasco ayuntamientos diputación foral de álava y gobierno de españa además

mediante encomienda de gestión y por tanto adelantando su financiación las obras de los accesos a bilbao en el tramo del túnel zaratamo a cantalojas

para ayudar también que se pueda agilizar la ejecución de esas obras mire señora larrea

de este gobierno en el desarrollo del tren de alta velocidad en euskadi y esta afirmación hace referencia al gobierno de españa

usted y yo hemos tenido oportunidad de debatir en otras ocasiones este asunto y le demostrado con cifras que esa falta de voluntad siempre coincide o casualidad con los momentos en los que su partido el partido popular

el volumen de las inversiones realizado por los distintos gobiernos a lo largo del tiempo no engaña no engaña y revela quién ha tenido la voluntad política de impulsar el proyecto y quién no

esta es la realidad los cuatro últimos años el gobierno socialista rodríguez zapatero entre dos mil ocho y dos mil once el gobierno de españa

por el contrario los cuatro últimos años con el pp y rajoy al frente entre dos mil quince y dos mil dieciocho la inversión apenas superó los doscientos sesenta y seis millónes de euros esta es la realidad

cuando la inversión vuelve a mostrar una clara tendencia ascendente de hecho las partidas contempladas en el proyecto de presupuestos generales del estado para dos mil veintidós para la y vasca ascienden a más de trescientos millónes de euros

está claro que lo que nos dicen los datos es que para que avance adecuadamente la inversión necesaria para acometer las obras y las de la y vasca

es que siga habiendo un gobierno de españa con presidencia socialista señora larrea

señora larrea soy consciente de que la y vasca es una infraestructura de gran magnitud

que no avanzan al ritmo que nos gustaría pero estamos trabajando y poniendo todo por nuestra parte para que en esta legislatura se produzca un impulso significativo

en resumen y por despejar todas sus dudas uno

y bilbao serán soterradas dos el gobierno vasco se encargará de la ejecución de parte

y también parte del nudo de arkaute tres las soluciones que se puedan adoptar para poner en marcha el servicio mientras se ejecutan los soterramientos

ni retrasos ni cuestionamientos en los soterramientos y por último señora larrea

porque se la leo la tengo aquí y a propósito de verdades

una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo predicar como en su momento predicó la ministra ana pastor diciendo que

lo dijo en el quince dos mil quince el año de menor inversión del tav en euskadi o el ministro de la serna que en el dieciséis dijo que

y en el diecisiete la inversión no solo subió sino bajo usted

de alquileres de lo básico y lo fundamental para las personas jóvenes de este país vamos a hablar de incapacidad de emanciparse por la incapacidad que ha tenido este gobierno a la hora de aplicar

con los alquileres por qué no nos sirve lo que se está haciendo por qué necesitamos políticas públicas de alquileres fuertes novedosas

diez mil jóvenes bilbaínos con trabajo quieren independizarse pero no pueden pagarse un piso edo el diario vasco ren azken titularretako bat

es una de las líneas estratégicas de mi departamento y también de este gobierno

todo nuestro empeño también recursos de los que dispone esta administración

en esta cámara gaztelagun es un programa de apoyo a la emancipación juvenil que pusimos en marcha el año dos mil diecinueve

pero que como también he manifestado en este foro hemos ido adaptando y mejorando progresivamente para incrementar su efectividad y su capacidad de respuesta

por ello ya en el diecinueve se decidió ampliarlo a demandantes con mayores ingresos para dar respuesta a la dificultad del acceso al alquiler libre en los municipios donde la vivienda presentaba una mayor carestía

de ser un programa temporal de ayudas para tres años

con ayudas que serán permanentes hasta los treinta y seis años tal y como señala el informe publicado por el observatorio de vivienda en diciembre del veinte

ayudas activas no obstante en los dos primeros años

mil novecientos noventa y dos jóvenes disfrutaron en algún momento de estas ayudas y a día de hoy según datos aportados por la sociedad pública alokabide esta cifra se ha superado situándose en dos mil cien los jóvenes a los que el departamento de vivienda ha ayudado a pagar el alquiler de su vivienda desde el nacimiento de gaztelagun el rumbo señora saez

está siendo efectivo y además va avanzando en los objetivos que nos propusimos con su puesta en marcha es más nuestra intención nuestros objetivos de cara al próximo año veintidós

beneficiarias a través del impulso a esta iniciativa del gobierno y sí ciertamente

ha modificado las rentas máximas de las viviendas del programa asap

de este modo en lo que a este último programa se refiere

la renta mensual de las viviendas se ha visto modificado el límite de los precios de los alquileres establecido para este programa límite que

y en vitoria gasteiz a los setecientos cincuenta en las áreas metropolitanas de bilbao donostia san sebastián y los municipios de más de

y a los seiscientos setenta y cinco euros en el resto de municipios pero dice más la orden dice que

las personas que en anualidades posteriores a la inicial

veintinueve barra mil novecientos noventa y cuatro de veintinueve de noviembre de arrendamientos urbanos qué hemos pretendido con esto pues mire adecuarnos a la realidad en la medida de nuestras posibilidades ya que como bien sabrá gestores de lo que si se me permite coloquialmente se conoce como cosa pública es decir

que en todo caso siempre son limitados y en consecuencia estamos obligados a priorizar el destino que les damos a los mismos y además nos preocupa e intentamos evitar que las ayudas públicas pudieran contribuir

como es el incremento de los precios en las viviendas de alquiler de hecho las modificaciones introducidas en el programa han permitido incrementar de forma importante el número de personas jóvenes que reciben ayudas para el pago del alquiler en el año veinte

una ayuda que a fecha de hoy supone el cincuenta y uno por ciento de la renta que abonan los perceptores que perciben una cuantía media por beneficiario de doscientos diecinueve euros aunque

de doscientos cincuenta euros quiero también adelantarle que vamos a intensificar nuestra apuesta en esta materia conciliando el

con el programa gaztelagun por lo que

está fijado otra cosa es que como siempre desde el departamento estamos abiertos a considerar la oportunidad y conveniencia

lo hemos hecho y no renunciamos

este es uno de los asuntos prioritarios en el departamento que dirijo

a la problemática del acceso a la vivienda en alquiler entre las personas jóvenes y por eso precisamente nació este programa

usted sabe pionero en españa sabemos y conocemos la magnitud del problema

es un reto para nosotros en este mismo sentido el fomento del alquiler asequible es una de las apuestas y prioridades

con la vista puesta también en los jóvenes nuestro propósito es facilitar y garantizar el acceso a una vivienda digna

para realizar y desarrollar un proyecto de vida lo más pleno posible y entre ellas cómo no a las personas jóvenes trabajamos incrementar y mejorar el parque de vivienda de protección pública y para asegurar el derecho a una vivienda digna y adecuada centrando

en la consecución del más amplio parque de vivienda de alquiler posible esta ha sido nuestra apuesta la mía personal y la de los socialistas vascos y así quedó constatado en la ley de vivienda

en el año dos mil quince las líneas y las estrategias que persigue este gobierno

está marcado y bien orientado y no solo porque lo dice la ley de vivienda sino también porque este gobierno ha lanzado iniciativas de calado como ha sido y es

ayudar a las personas jóvenes y su proceso de emancipación va a seguir siendo una de nuestras prioridades

postre pertenecen a toda la ciudadanía que debemos de priorizar en ese sentido

y que la problemática sobre la vivienda que afecta a la juventud como le he dicho es una de nuestras prioridades pero creo

sino también para el resto de administraciones que operan en nuestra comunidad autónoma con competencias en materia de vivienda además de las sociedades municipales de vivienda y otros agentes

a todos los actores públicos y también a los privados

la situación como hace usted conocemos de primera mano la situación de la juventud en euskadi

y el oído puesto para escuchar estudiar acordar y programar de manera constructiva soluciones en esta materia como comprenderá

y en lo que se refiere a la juventud menos aun nosotros ya damos pasos

su interpelación en sí misma es una muestra más de que lo estamos haciendo podría hacerse más seguramente queremos hacer más también y en eso estamos señora saez de egilaz en este sentido estamos acompañando

de alojamientos dotacionales especialmente destinados al colectivo joven

hemos establecido un cupo de hasta el cuarenta por ciento en las adjudicaciones de viviendas de alquiler expresamente dirigido a las personas jóvenes y nuestra intención a corto plazo es extender este cupo joven también el programa bizigune en lo relativo a la cuantía de las ayudas propiamente dichas para el próximo ejercicio dos mil veintidós

a las personas jóvenes pero como ve nuestra ambición nuestros propósitos como decía van más allá que el conocido programa

de cómo planteamos las políticas de emancipación o las políticas para los jóvenes en general no estamos hablando de ayudar a la juventud no estamos hablando de echarles una mano en una situación concreta estamos hablando de cómo vamos a hacer para que todos los derechos de todas las personas

debatiendo discutiendo y sobre todo eso es lo que queremos lograr eta uste dut kasu honetan adibidez gazteak laguntzaz askoz haratago goazela

concreto sino de adecuarnos a la realidad con todas las políticas públicas que tenemos y si hay que crear otras pues se crean otras en estos momentos estamos intentando decir intentando también gritar creo y desde la calle se está diciendo que no es suficiente lo que se está haciendo porque existe un mercado privado de alquileres donde todo el mundo está diciendo que esos alquileres están llegando a un tope a un record en el que no podemos asumir

asumir tenemos que plantear otras alternativas y tenemos que decir que ya vale que aquí las cosas no funcionan así

izan beharko gara edo izan beharko da behintzat sail hau porque creemos que de verdad es muy difícil el hecho de vivir en alquiler y tenemos que plantear

soluciones dignas para estas personas que viven en alquiler y tenemos que blindar todos esos derechos para que la gente pueda vivir en alquiler y sea una solución real una alternativa

gracias presidenta señora saez de egilaz mire usted los problemas de la juventud son y serán muchos no tengo ninguna duda pero a mí me corresponde

y plantear las medidas que considero más apropiadas dentro de las capacidades de gestión de mi departamento y dentro de los instrumentos de gestión y planificación que manejamos con vistas al futuro

tendremos la oportunidad de debatir en esta misma sede la misión principal del plan

a las personas con necesidad de una vivienda digna y adecuada incrementando la oferta de recursos destinados

como a la mejora de las condiciones de habitabilidad y sostenibilidad del parque residencial

reforzar la apuesta por la promoción del alquiler protegido de iniciativa pública y privada incorporando nuevas fórmulas alternativas de acceso a la vivienda de alquiler asequible es otra de las líneas de actuación del plan director de vivienda

de la necesidad de vivienda de las personas jóvenes en este marco general de actuación previsto para los tres próximos años las personas jóvenes como le digo pero también otros colectivos necesitados de vivienda van a tener un papel preponderante con este fin el plan contempla toda una línea de ayudas incluyendo la rehabilitación y adquisición de conjuntos residenciales a través de cooperativas y otras formas

la cesión de las viviendas deberá tener como personas beneficiarias a personas jóvenes personas mayores

así como a aquellos colectivos en los que se justifique fehacientemente la necesidad de vivienda las promociones podrán dirigirse a uno o varios colectivos en una misma promoción este es un

sobre la que trabajamos para dar respuesta a las necesidades en materia de vivienda que se dan en nuestra comunidad

requiere enfoques particulares como es el caso de las personas jóvenes

de este bien de primera necesidad y para conseguirlo tenemos que trabajar en conjunto colaborar y cooperar todos los agentes implicados tanto públicos como privados este un tema que nos afecta a todos y también a la sociedad civil en su conjunto

todo ese marco de cooperación queremos instrumentarlo mediante un pacto por la vivienda en el que ya estamos trabajando y queremos hacerlo lo más participativo posible y queremos

hacer propuestas concretas más allá de la reivindicación general propuestas concretas

si son posibles porque a veces

este foro en esta tribuna hacer grandes propuestas generalistas y reivindicativas

y que permitan a la gente pasar de la expectativa

que es poder desarrollar su vida en una vivienda digna

lo hicimos antes lo hicimos antes me correspondió también a mí

y ahora lo queremos hacer y lo volveremos a hacer como ve señora saez de egilaz la falta de orientación de rumbo no es algo que nos preocupe

sabemos dónde queremos ir pero también sabemos que esta travesía no la podemos hacer solos si lo que se pretende es llegar a buen puerto

la necesidad de muchos de nuestros conciudadanos que necesitan de una vivienda digna y para eso

unir esfuerzos cada uno desde su responsabilidad desde su sitio pero sin olvidar que

gara momentu honetan una nueva herramienta que se va a poner en marcha gracias a la nueva ley de vivienda que se va a aprobar en el conjunto del estado y por tanto también se va a poner en marcha aquí

defensa de la vivienda y de defensa de las inquilinas y gracias también a la presión de unidas podemos vamos a tener esa ley de vivienda a nivel estatal

la respaldamos la mayoría la defendemos y además defendemos que se profundice y que tenga más presupuesto lo que va a traer

más competencias y más capacidad de intervención en el mercado behin baino gehiagotan

que no se podía que no había competencias para regular en euskadi el mercado privado del alquiler pues bien ahora

diputados va a permitir sí se va a poder regular el mercado privado del alquiler y usted

en otra interpelación que estaba pidiendo y reclamando medidas y propuestas concretas pues bien en el día de hoy y a través

aquí traemos una propuesta concreta desde elkarrekin podemos izquierda unida hemos peleado para que euskadi y el conjunto del estado tenga esta nueva competencia

una regulación de los precios del mercado privado del alquiler y citando también al lehendakari en la mañana de hoy lo importante en un gobierno

es la relación pero sobre todo el sentido práctico que tiene lo hemos demostrado en el estado y eso es lo que le pedimos también al gobierno del pnv psoe aquí usted acaba de decir también que está abierto

y propuestas concretas por tanto hoy a través de esta

de ley a partir de lo aprobado en ese anteproyecto de ley se pueden declarar zonas tensionadas del mercado de vivienda y se pueden tomar medidas extraordinarias para

en los alquileres que están en manos de los pequeños propietarios y además se propone un sistema de incentivos fiscales para animar a esos pequeños propietarios a bajar

en euskadi y que la mayoría como vuelvo a decir respaldamos y se van a poder bajar los precios en las viviendas de los fondos

tenedores es decir en los que tienen más de diez viviendas seguramente a mi grupo parlamentario

nos hubiera gustado que la ley de vivienda fuera todavía más allá

tenemos una nueva competencia que euskadi puede usar que se pueden declarar zonas del mercado residencial tensionado en el artículo dieciocho de ese anteproyecto de ley cuando los gastos del alquiler y de los suministros básicos superen más del treinta por ciento de los ingresos de una unidad familiar

adquiera unos límites establecidos en esa ley y cuando además los poderes públicos como pasa ahora porque no tenemos el suficiente parque de vivienda público

social no puedan satisfacer esa demanda ahí se van a poder tomar esas medidas extraordinarias

se mejora también la protección contra los desahucios y espero que también esas mejoras se apliquen aquí en euskadi a través del papel del gobierno vasco y de ese convenio también con el poder judicial y con los servicios sociales municipales por tanto usted reclamaba

el gobierno vasco en el sentido de regular el mercado privado del alquiler eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna arriola jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta señor martínez efectivamente el pasado martes

junto con el ministerio de derechos sociales y agenda dos mil treinta presentaron el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda al consejo de ministros

en primera lectura se trata de un primer paso que da inicio a una tramitación previa a la conformación de un texto final

a las cortes generales se trata de un anteproyecto de ley

primero porque el hecho de que se haya llegado a un acuerdo en una materia tan sensible como la vivienda un acuerdo que puede dar lugar tras su tramitación parlamentaria a la primera ley de vivienda

es en sí misma una buena noticia y segundo porque es bastante evidente

distintas medidas inspiradas por las políticas de vivienda que ya estamos desarrollando en euskadi como recordará este paso ya lo dimos en euskadi en junio de dos mil quince cuando aprobamos la ley vasca de vivienda

impulsada por los socialistas que ha servido de referencia en muchos aspectos

de españa y que en otros de gran relevancia como el reconocimiento del derecho subjetivo

usted me interpela sobre las intenciones del gobierno de cara a regular el mercado de alquiler

años interviniendo en el mercado de la vivienda de alquiler a partir de la conjugación de distintas medidas que actúan simultáneamente sobre la oferta y la demanda por cierto también el anteproyecto de ley de vivienda de españa

de forma integral desde que se transfirieron las competencias

y desde dos mil tres todas las viviendas protegidas que se construyen conservan la calificación de vivienda protegida de manera permanente este decisivo paso ha propiciado que dos de cada tres

existentes hoy en día en euskadi tengan ya la calificación permanente por lo que mantendrán su función social

su vida útil el anteproyecto de ley no llega a tanto se fijan a nivel estatal unas condiciones básicas definiendo un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se sobre el suelo calificado de reserva y en el resto de los supuestos se fija un plazo mínimo de descalificación de treinta años

además en euskadi se obliga por ley a los ayuntamientos a reservar el cuarenta por ciento del suelo urbano

para la construcción de vivienda protegida esto significa que del suelo disponible para edificar en el futuro que se sitúa en torno a las ciento ochenta mil viviendas más de ochenta mil llegan a ser de protección pública

el anteproyecto de ley española establece la posibilidad de que la legislación urbanística pueda establecer una reserva de treinta por ciento

pero el verdadero hito de la política de vivienda en euskadi ha sido como le he comentado anteriormente

de dos mil quince que determina la función social de la vivienda somos la primera y una de las pocas comunidades junto con navarra y baleares

si carecen de los recursos económicos necesarios para conseguir una este salto cualitativo ha convertido el acceso a una vivienda digna en un derecho reconocido por la ley de rango similar a la sanidad la educación o la atención a la dependencia

optando preferentemente por el alquiler social

este derecho subjetivo se encaminan todas las medidas que adoptamos por el departamento en especial el incremento del parque público de alquiler a través de la nueva edificación y la captación de viviendas deshabitadas en euskadi como usted sabe disponemos de un parque público de alquiler que ha superado ya la cifra de veinticinco mil viviendas

hay que recordar también que el veintinueve por ciento de las calificaciones provisionales de vivienda protegida en alquiler de toda españa corresponden a euskadi

en alquiler además hemos intensificado nuestra apuesta por movilizar el stock de vivienda vacía a través

especialmente el programa bizigune que cuenta ya con más de seis mil ochocientos viviendas se estima

residen en una vivienda de alquiler y que más de la mitad de ellos cuenta con un alquiler intervenido públicamente bien porque reside una vivienda con precio protegido o porque tiene ayuda para el pago del alquiler hay otras cuestiones importantes en el anteproyecto como la mejora de la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad para garantizar

entre el órgano judicial y los servicios sociales en euskadi

tenemos en marcha un convenio con el consejo general del poder judicial y los servicios sociales de base de los ayuntamientos que realizan esta labor solo un dato

ocho años el número de lanzamientos en euskadi ha pasado de

y somos la comunidad con el menor volumen de lanzamientos por habitante de españa

así como un refuerzo de las actuaciones en materia de rehabilitación cosa que también estamos haciendo aquí y en lo que respecta a la regulación de precios el anteproyecto establece un mecanismo de carácter excepcional y acotado en el tiempo

para intervenir en el mercado a través de varias líneas de actuación se está hablando por una parte

de fijación de topes para particulares y grandes tenedores

y cómo se habilita a las comunidades autónomas y entidades locales para llevarlo a cabo en el caso de que

usted sabe que el problema fundamental de euskadi en esta materia es la falta de oferta de vivienda

a ver en qué y cómo nos faculta por cierto

en precios razonables en línea con los índices de referencia de euskadi y penalizar a aquellos que disparan

esta propuesta se presentó en su día ante el órgano de coordinación tributaria

porque esta es una cuestión nuclear que puede ayudar y mucho

de los alquileres en todo caso entendemos que la ley va a servir para ayudar a clarificar el escenario al establecer un marco regulatorio hasta ahora inexistente que sirva de paraguas legal a las comunidades autónomas

en materia de vivienda y que abra nuevas posibilidades de actuación si así
lo estimamos necesario muchas gracias eskerrik asko arriola jauna

de las políticas que ha citado ya lo he dicho al principio de una forma muy resumida digo para que se vuelva a entender que respaldamos la mayoría de las políticas que se están llevando a cabo de vivienda en euskadi y que además como usted sabe bien aunque luego no lleguemos a acuerdos en materia presupuestaria que todos los años

de vivienda enmiendas además también para dotar de más personal al departamento de vivienda y que generalmente el que pone problemas para aumentar las partidas de vivienda

no es nuestro grupo parlamentario precisamente sino que es el socio mayoritario de este gobierno por tanto

en el día de hoy queremos hacer ver con esta interpelación es que ese anteproyecto de ley ahora mismo tiene un artículo dieciocho en el que se regulan cómo se van a desarrollar las declaraciones de las zonas de mercado tensionado de vivienda de alquiler que es

de congelación de precios y de bajada de precios en el caso de los grandes tenedores por tanto la interpelación sigue siendo la misma

podamos llegar a un acuerdo porque pensamos que el gobierno vasco tiene las herramientas suficientes para poner los trabajos en marcha para hacer los estudios técnicos necesarios

regular para declarar esas zonas de mercado tensionado para que en el momento que esa ley entre en vigor y euskadi tenga una nueva competencia euskadi sea más soberana para poder intervenir en el mercado

de una forma mucho más efectiva el derecho subjetivo a la vivienda que tenemos reconocido en euskadi y por tanto no hagamos perder el tiempo y lleguemos a tiempo para que cuando esa ley esté en vigor podamos aplicarla desde el minuto uno

que a todas luces con todas las estadísticas que tenemos en la mano las del gobierno y otras estadísticas cumplen los requisitos fundamentales para que sean declaradas como zonas

en el caso de las viviendas de los pequeños propietarios y se puedan bajar incluso también

señor martínez en primer lugar decirle que usted lo sabe la ley va a ser facultativa no impositiva

dele tiempo no quiera correr más que la propia tramitación parlamentaria de la ley

presentación de una moción antes de que saliera ni siquiera a hacer

y en segundo lugar no pretenda que a estas alturas de mi vida empiece a hacer política de trazo grueso

la solvencia de euskadi en política de vivienda es precisamente ese que hemos logrado

de efecto y hemos conseguido conjugar una política coherente la promoción de nueva edificación y la captación de vivienda vacía un sistema amplio de prestaciones económicas y la elaboración de normas que incentivan la puesta en alquiler

de forma reiterada euskadi cuenta con una cobertura social en materia de vivienda que no tiene parangón en el resto de españa y eso no ha convertido en un referente para el resto de comunidades autónomas y también

de españa a la vista de los contenidos del borrador que conocemos

del desarrollo de políticas de vivienda específicas y contextualizadas

es la escasez de oferta también

apenas supera el doce por ciento y que los propietarios arrendadores son en su gran mayoría particulares personas que se han hecho con la vivienda en la mayor parte de los casos gracias a su trabajo

pero no se equivoque no entienda con ello que no valoramos el anteproyecto de ley del gobierno de españa al contrario estamos convencidos de que es absolutamente necesaria una ley de vivienda estatal

en todos sus extremos a las comunidades autónomas y entidades locales sobre todo en materia de regulación de precios asunto en el que como sabe

por eso le aseguro que seguiremos con mucha atención la tramitación del proyecto y estudiaremos con detenimiento su concreción

si la situación del mercado en euskadi lo requiere en este sentido puedo anunciarle que el próximo plan director de vivienda

el documento que recoge las líneas estratégicas de la política de vivienda en euskadi para los próximos años va a incluir en su contenido el estudio y en su caso implementación teniendo en cuenta la situación de la oferta de viviendas de alquiler en euskadi de las medidas propuestas en la ley estatal de vivienda aplicada a los grandes tenedores

este proyecto de ley en el congreso en el fondo creo sinceramente que usted y yo estamos de acuerdo en muchas cosas

de las que usted piensa que compartimos objetivos y buena parte de la filosofía que

una filosofía que no persigue otra cosa que mejorar las condiciones

también creo que el margen de mejora por eso señor martínez

de mejora en la negociación de los presupuestos que comenzará en breve a hablar con este gobierno y acordar medidas que nos permitan seguir profundizando en el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía muchas gracias